por cierto estaré encantada de escuchar los argumentos que puedan tener ustedes en contra de esta pretensión tan básica y tan humana que es la de gobernarse a sí mismo

gogoak ematen dielako no es porque crean que ellos lo hacen mejor saben que no que lo hacen mucho peor

nos va mucho mejor es porque tienen una idea imperial del estado anteponen la unidad de españa sobre cualquier otra consideración y como les he recordado en alguna otra ocasión con esta idea han pasado de que no se pusiera el sol en el imperio en tiempo de felipe cuarto a que el sol

en recorrer sus posesiones en tiempos de felipe sexto zauria baino lehen benda jartzen ari naizela esango didazue agian

han querido hacer un llamamiento a abandonar la indiferencia y a retomar el rastro de conciencia crítica por un nuevo estatus para euskal herria que nos otorgue competencias plenas y nos reconozca como pueblo como nación que es exactamente lo que somos hori da bidea

y ha venido para quedarse lo dije la semana pasada el artículo ciento cincuenta y cinco no es un artículo de quita y pon

se encarcela a raperos a quien pide el fin de la dispersión a quien se enzarza en una pelea

y es la hora de abrir los ojos qué más necesitan los que aún dudan para verlo claro

no al ciento cincuenta y cinco pero tampoco a la declaración de independencia

ante el hecho de la nueva estructuración del estado español después de afirmar los derechos naturales e históricos

con las demás repúblicas ibéricas y señores del partido popular señores del partido socialista se han convertido ustedes ya en el principal problema zuen itsukeriak

y las vergüenzas del estado que representan están quedando en evidencia ante todo el mundo son ustedes los representantes del no

y política de este país y cada vez más menguaditos pues retuercen la ley manipulan la justicia

lo hacen dejando a la vista ante europa y ante todo el mundo diría las vergüenzas del estado que ustedes han construido un estado que lo decía antes sigue intentando envenenar a la sociedad vasca

descaradamente inventándose violencia en cataluña que es capaz de decir que pitar un

esto por no hablar del bochorno que supone que todo un tribunal supremo como un niño al que le han quitado la pelota ponga a parir a jueces alemanes en un auto que solo debía resolver

de investidura solo debía resolver eso y ya ven ustedes y es que me parece que incluso para hacer amigos señoras y señores del partido popular y del partido socialista

nos parece que en todo caso la historia les va a pasar por encima salvo que rectifiquen sobre todo ustedes señores del partido socialista porque muchos de sus militantes los de ahora y los del pasado

el partido que un día supo hacer de la libertad su bandera

hace ochenta y siete años que en itsasondo toda su corporación donde por cierto

aprobó una solemne declaración en la que reclamaban como primer acto de autodeterminación del país vasco la proclamación de la republica vasca confederada con las demás republicas ibéricas piénsenlo señores del partido socialista piénsenlo de verdad y ordenen sus prioridades

decidan qué está por encima de qué autogobernu ponentzian ez dago oraindik erabakirik baina ikusi daitezke

inoiz gustatuko como tampoco vale otorgar derechos de veto en nombre

hablándoles de derechos sociales mientras se decide dejar el mango de la sartén a los de siempre

el núcleo y clave principal en el que está trabajando para la actualización del autogobierno es el modelo de relación de este país con el estado español

así reza la justificación de la moción que hoy euskal herria bildu ha traído a este debate al parlamento sinceramente ese es el núcleo o sea a mí permítanme que lo dude permítanos que lo dudemos

no sé si calificarla como obsesión o como obcecación

en elkarrekin podemos creemos que la clave principal del debate de autogobierno es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca y esa calidad no se garantiza por ser independientes o confederales que puede ser nuestra propuesta o una comunidad autónoma se garantiza si el acuerdo al que llegamos

incluye garantías para acceder a un empleo digno a una salud o a una educación pública de calidad si se blinda la garantía de ingresos

y no no creemos que este dilema se resuelva en tener que elegir u otra derechos sociales o estatus jurídico no creemos que sean excluyentes eso es una mentira es una simplificación vacía tan vacía como el intento de estar día sí y día también hablando una y otra vez del estatus pero no de las cuestiones que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía vasca porque sinceramente no es tan difícil

a nuestro carácter nacional como a lo social pero la pregunta o lo que yo me pregunto por lo menos es por qué sus iniciativas incluida la de hoy nunca aparece o tiene la misma importancia

por qué las cuestiones sociales cuando aparecen si es que lo hacen porque hoy ni se las cita hoy ni se las cita lo hacen en un plano secundario

y nosotros claro que estamos en claro que estamos en la calle efectivamente

porque hoy el grupo que va a estar aquí defendiendo el blindaje de los derechos sociales somos nosotros no ustedes

que las decisiones que tomemos en este parlamento y que tome la ciudadanía vasca tienen que ser respetadas del mismo modo que no tenemos inconveniente alguno en decir

por más tiempo planteando que lo único que se va a decidir en este país es la cuestión territorial porque no es verdad

y no es verdad porque no separable la construcción nacional de la construcción social

un determinado modelo social y cuando una y otra vez

lo social lo que se está diciendo es que algunos están dispuestos a aceptar cualquier modelo de construcción social siempre que la parte nacional le satisfaga

y que lo social resulta secundario y que es lo nacional lo que se prioriza a todas luces

y frente a este punto de vista nosotros desde luego estamos convencidas de dos cosas la primera y esto es un aviso a navegantes también

en torno a cuestiones como educación pública garantía de ingresos etcétera sin duda

pero ojo con quien crea que va a ser más sencillo acordar en esto o acordar en lo territorial

la sociedad vasca necesita de todo menos frentes

hoy la sociedad vasca quiere un acuerdo plural amplio y transversal y sí ese acuerdo será tan ambicioso como la propia

y si esa decisión y sí efectivamente esa decisión deberá ser respetada y esa decisión habrá que defenderla pero hoy lo que se plantea es otra cosa hoy se busca una foto entre pnv y bildu porque si no

una foto en la que uno se conforma con esa priorización nacional sobre lo social en la que otros blanquean su imagen

de perlas hoy esta iniciativa

muy tranquilo el mismo día en el que están negociando en madrid con el partido popular

se sacan una foto que calma a su sector más soberanista hoy el mismo día que están dando oxígeno en madrid al partido popular

al de las amenazas de recurrir las cuentas vascas pueden llenarse la boca hablando del derecho a decidir hoy

lo que no tenemos nada claro es si a la izquierda de este país le viene tan bien

esta cortina de humo este blanqueamiento de los pactos del pnv con el pp le viene bien ni a ella

y qué alternativa hay ante esto una alternativa muy sencilla que es la que planteábamos en nuestra enmienda

al mismo tiempo que se pone en valor los aspectos sociales del nuevo estatuto al que aspiramos ni más ni menos

entonces lo que yo me pregunto hoy es por qué hoy ya no vale el acuerdo que se hizo hace un año más aún qué gana la ciudadanía vasca hoy con este acuerdo

el respeto a la voluntad democráticamente expresada de la ciudadanía vasca que lo que se va a aprobar hoy nosotros creemos que no pero sin duda lo que es la iniciativa que se debate hoy es menos social que la que se debatió en dos mil diecisiete más aún es social hoy en este acuerdo no se cita nada de lo que sí se decía hace un año hace un año se decía y cito literalmente que había que hacer

se decía que había que garantizar la solidaridad intergeneracional esto es las pensiones hoy todo esto la parte social desaparece y a cambio no se gana

insisto qué gana hoy la ciudadanía qué ganan quienes impulsan este acuerdo esa es la gran pregunta que hay que resolver hoy más aún remitirnos al acuerdo de hace un año sumaba a la práctica totalidad del arco político

reduce este acuerdo a dos partidos nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva no vamos a dejar no vamos a apoyar políticas de frentes no vamos a sumarnos

del mismo modo que no vamos a admitir ni consentir los vetos que se esgrimen desde psoe o pp para no avanzar en las decisiones que tomemos ni en esta cámara

y sinceramente en elkarrekin podemos estamos totalmente convencidas de que las claves

ni frentes ni vetos ni acuerdos que marginen los contenidos sociales son las claves que creemos que quiere una amplísima mayoría de vascos y vascas la de hoy desde luego es una oportunidad perdida para un acuerdo así

comprometido con las decisiones de la sociedad vasca y con la mejora de la vida de la ciudadanía

bien buenos días yo le quiero reconocer a la señora iriarte y a su grupo la habilidad para conseguir hablar todas las semanas de cataluña
sea con la excusa que sea casi se ha convertido usted en el coaching de los independentistas catalanes verdad

para que discutamos de garantías democráticas sobre lo que hacemos en este parlamento y en fin como definición pues no puede más que decir que la compartimos completamente pero en su conclusión discrepamos completamente yo le quiero decir al señor martínez que tenía usted excesivas esperanzas

estrategia electoral de bildu ha sido siempre la misma lo identitario y lo territorial por encima de todo lo demás y esto es exactamente una muestra palmaria de ese discurso

la profundización del autogobierno que contempla las garantías democráticas plenas lo hemos repetido en la ponencia de autogobierno muchas veces acuerdo político y respeto a la voluntad ciudadana y al ordenamiento jurídico vigente que quiero recordarles a ustedes que aparece en el acta de constitución de la ponencia de autogobierno en la que ustedes participan

eso es la democracia aceptar la voluntad ciudadana respetando los procedimientos que esa misma voluntad ciudadana a través de su representación legítima ha acordado todo lo demás son atajos que tienen mucho de propaganda pero poco de democrático de verdad

hay unas cuantas fases de la historia de los últimos cuarenta años que se les han debido

por dos veces se nos quiso recordar con razón que una parte de la actual bildu

pero desde luego sí quien fue su presidente y el lehendakari de todos carlos garaikoetxea voy a remitirme a las reglas lehendakari pactó porque igual que alguien quiere borrar episodios o romper viejas fotos pues a nosotros nos gusta conservar con mucho orgullo aquella de la casilla

ramón rubial compartieron la alegría del inmenso respaldo

un estatuto con ese empuje popular y con unas reglas claras sobre cómo reformarlo léanselas están en su artículo cuarenta y seis

y reconocemos la parte que nos toque de los incumplimientos se lo reclamamos al gobierno de españa y se lo reclamamos

que exija cumplir la ley estatutaria en cataluña y que no la cumpla en euskadi con igual motivo reprochamos a quienes un jueves

y al jueves siguiente nos pide que nos la saltemos en eso estamos en la ponencia de autogobierno una ponencia que nace del mandato parlamentario del veintiséis de enero del pasado año que dice literalmente que la ponencia establecerá o acordará la formula o procedimiento más adecuado para la elaboración de un borrador de texto articulado

respetando el ordenamiento jurídico línea que ustedes borran de su

la actualización y renovación del autogobierno como oportunidad para que una mayoría amplia y plural de vascos y vascas renueve el pacto político y social

y futuros el autogobierno entendido en un sentido amplio contemplando entre otros aspectos la consolidación y extensión de los derechos sociales económicos o culturales la solidaridad intergeneracional el diseño de la arquitectura institucional interna de euskadi con nuevas formas de relación entre las instituciones y la ciudadanía asimismo

y por supuesto que nosotros lo hacemos la voluntad política democráticamente expresada por la ciudadanía vasca la que nos exprese sobre una propuesta que los grupos seamos capaces de acordar

ese mismo ordenamiento que es el que hace posible que hoy estemos aquí hablando de esto el mismo que nos confiere a todas y cada una de las personas también a usted

nuestra propia legitimidad como representantes de la ciudadanía por eso este parlamento

en lo que haga como lo será seguro un gobierno donde estemos sentados los socialistas de hecho así nos comprometimos a hacerlo expresamente cuando se suscribió el acuerdo que ha permitido centrar la agenda en las preocupaciones de la ciudadanía en sus problemas y en ofrecer soluciones

de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes con el propósito de profundizar en la convivencia democrática y avanzar en la cohesión y en la justicia social

a las que se encomiende la redacción del articulado tengan en cuenta las experiencias fallidas anteriores las que cita el grupo proponente hoy

de cataluña porque en ambas el problema no será la voluntad mayoritaria el problema era que desde un texto estatutario

encubierta algo que nosotros hemos preconizado que se puede hacer y que ustedes

sobre ese asunto como se explicaba de forma gráfica en un reciente artículo

esto del derecho a decidir que ustedes plantean no es como regular un divorcio una relación entre dos es mucho más parecido a decidir si mañana haces obras en tu casa

y para hacer eso se requiere la opinión del conjunto de los vecinos de la comunidad de todos ellos pues aquí también necesitamos la opinión del conjunto de vecinos y vecinas de ese edificio que decidimos compartir y que se llama españa vocablo que ustedes hacen desaparecer de su vocabulario ese edificio que a través de nuestro estatuto pactaron en representación de la ciudadanía vasca garaikoetxea arzallus rubial o benegas

pero que en su arreglo no puede llegar a desahuciar a nadie

queremos que se tenga en cuenta que el proyecto de convivencia y cohesión

los procedimientos la legalidad el diálogo y el consenso son tan importantes por lo menos como los contenidos porque lo que queremos entre otras cosas es plena seguridad

en la que el victimismo campa por sus anchas y en las que se deja a una mitad de la población estupefacta de lo que están haciendo quienes deben resolver sus problemas y es desde ahí donde queremos que el nuevo pacto reconozca la pluralidad y entidades y sentimientos que existen en la sociedad vasca no van a desaparecer

incluso al embate terrorista y que se propone definir con claridad las obligaciones de los poderes públicos para garantizar los derechos a la salud a la educación a la protección social

a la transparencia y a la participación en la gestión de los recursos públicos esa es nuestra propuesta eso es lo que vamos a seguir proponiendo

con plenas garantías democráticas de respeto a las mayorías y a las normas que hemos acordado un pacto de convivencia viable

vamos a seguir empeñados y confiamos además en que sea posible llegar a ese acuerdo

lehendakari jauna señores y señoras consejeros y consejeras egun on guztioi

sorpresa o perplejidad que está despertando esta iniciativa suya

del constitucionalismos defendiendo el estatuto de autonomía y hoy pretenden que sin solución de continuidad cambiar de discurso y ser los aladies de que salte por los aires bueno alguien podría decir que vuelven ustedes al redil

parece más lógico es que vuelven ustedes a intentar remover de una manera artificial un debate que se está produciendo

en el seno de la ponencia de autogobierno hasta la fecha pero que sigue su cauce y sigue

la realidad es que hace poco más o menos seis años decidimos esta cámara decidió constituir la ponencia de autogobierno para reflexionar para analizar por un lado el desarrollo estatutario y en función de ese análisis abrir un debate y una reflexión que pudiera derivar en un nuevo estatuto de autonomía otros lo han calificado como estatus jurídico bueno etcétera etcétera etcétera y

en que poco en claro hemos sacado lo que demuestra también por otro lado la dificultad que supone en esta cámara entre los grupos parlamentarios aquí representados y por lo tanto también entre los representantes de los vascos para encontrar un punto de anclaje y un punto digamos intermedio

algo de responsabilidad puede existir en una mayoría de grupos parlamentarios entendiendo la dificultad del debate y entendiendo también las derivadas negativas que equivocarnos y que profundizar en una senda de enfrentamiento

pero uno de los principios básicos en torno a los cuales hemos articulado ese debate uno de los principios básicos en torno al cual los debates se han producido en el seno de esa ponencia ha sido desde el primer momento primero porque lo dijimos negro sobre blanco y aquí se ha recodado pero porque también

así han insistido en ello en que en cualquiera de los casos en cualquiera de los casos ese debate el debate de la ponencia siempre desembocaría en un texto en su caso insisto con todas las prevenciones en un texto que respetara el ordenamiento jurídico vigente hasta aquí el acuerdo nos ha ido permitiendo

en algunas de las materias sobre las que se está debatiendo nos ha permitido ir bueno es verdad que

a la hora de la verdad este principio de aceptar el ordenamiento jurídico vigente a la hora de proponer una reforma en su caso del estatuto de autonomía pero nos ha permitido ir avanzando

que pudiéramos ir en un clima de confianza insisto exiguo pero un clima de confianza en virtud del cual las diferentes formaciones políticas no se sentían del todo incómodas pues el socio de gobierno del partido nacionalista vasco

pero al final se aceptará el ordenamiento jurídico a podemos tres cuarto de lo mismo

a la espera de que se pudiera alterar pero lo hemos

avanzando lo que no puede ser es que esto se convierta pase de ser

pase a ser algo que se mantiene o no en función de si me interesa

que desbordar la ley siempre es el principio de la tiranía de la tiranía del empobrecimiento del enfrentamiento

cuando ha articulado su convivencia en torno a la ley en torno a unas normas de las que nos hemos dotado para convivir entendiendo la pluralidad de esta sociedad entendiendo su dificultad y su complejidad

el marco del que nos hemos dotado es algo a preservar para evitar deslizarnos por un terreno y por un camino de enfrentamientos y

siempre y eso nos lo dice la experiencia desemboca en la tiranía pues bien hoy eh bildu pretende hacer saltar todo esto por los aires este principio entorno al cual hemos articulado insisto de una manera quizá

el principio del respeto del ordenamiento jurídico hoy eh bildu pretende hacerlo saltar por los aires

no nos sorprende demasiado

esto es lo que resulta verdaderamente sorprendente que ustedes vayan avalar esta proposición no de ley en virtud de la cual a través de una prospección no de ley se da carta naturaleza a la posibilidad de modificar la constitución española

insisto con el aval de una proposición no de ley aquí aprobada hoy que van aprobar ustedes les van a dar un argumento para en el futuro decir oiga que hay una proposición no de ley aprobada en el parlamento vasco que dice que puedo hacer de mi capa un sayo y que salga lo que salga de esta ponencia

jurídica y legal hay que respetarlo lo cual entenderá señor egibar que resulta verdaderamente preocupante

lo siguiente porque el resto de los argumentos parecen que ya son muy conocidos y manidos

si transitamos por esta senda de la inseguridad jurídica y por lo tanto también de la inseguridad política es aquí en euskadi donde se va a despertar el conflicto

por lo menos de paz social y política que se puede ver alterada de una manera seria y grave

sigan jugando con fuego y sigan jugando con algo que no vamos a permitir que es alterar que es romper que es perjudicar a euskadi a través del enfrentamiento que supone saltarse la ley

la ley también de la selva porque las consecuencias de esto de este juego

las consecuencias de esto pueden ser muy preocupantes mire

la sociedad vasca sabe muy bien que ni tan siquiera con pistolas ni con amenazas ni con bombas

no fueron capaces hoy una eta ya derrotada

y pretende el aplauso y el agradecimiento probablemente pero la realidad objetiva es que quisieron acabar con nuestra comunidad y con nuestra pluralidad hicieron mucho daño obviamente

eta ha hecho mucho daño a esta tierra pero no ha acabado con la pluralidad afortunadamente

su tabla de salvación y su enganche en el respeto a la ley

en esa esperanza de que siempre íbamos a tener la ley y el estado de derecho para proteger la pluralidad y la vida y el respeto a la convivencia y hoy es ese estado de derecho ese respeto a la ley el que ha vencido y el que ha triunfado

y nosotros estamos convencidos que hay que preservar ese respeto

aquí en euskadi pero también en comunidad con el resto de españoles y es algo

no les quepa ninguna duda y que se van a encontrar probablemente con muchos muros y probablemente para saltarse la ley y para cargarse la convivencia se van a encontrar

la principal y la más grande va a estar aquí en la propia euskadi que va a estar representada por el partido popular

decenas de miles de vascos que no quieren ver alterada la convivencia y que no quieren sentirse perjudicados en su propia tierra para terminar si algo

nos ha enseñado la experiencia en cataluña de lo que estamos viviendo

es que hacer reventar el ordenamiento jurídico es que hacer reventar las normas de las que se dotan las comunidades políticas

porque perjudica como les decía antes a la convivencia y no hay más que mirar hoy a cataluña también el clima de convivencia que existen entre los propios catalanes porque perjudica la economía

de una sociedad saltarse la ley no es inocuo aunque ustedes crean señores del partido nacionalista vasco aunque usted crea señor egibar que apoyar una proposición no de ley

y así vamos ganando oxígeno y ganamos tiempo para lo que sea es inocuo no lo es

y van ustedes facilitando y allanando un camino que no nos lleva a ningún sitio razonable y positivo

con lo que ustedes quizás crean que se puede hacer cálculos pero

no se puede jugar con la estabilidad institucional representada en esta cámara no se puede jugar con la estabilidad social la que existe en la calle por el clima de entendimiento y el progreso que hoy afortunadamente a diferencia sobre todo de cataluña existe en euskadi y si siguen por esta senda van a intentar

probablemente a ustedes a corto y medio crean que les resulte positivo políticamente

decenas de miles de vascos nos van a tener precisamente
en el otro lado en el de la convivencia en el del entendimiento y en del la convivencia entre vascos que piensan de manera diferente muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

hitzak dira respetaré y haré respetar

las obras cuando se hacen obras en un edificio las deciden sus vecinos pero no los del portal de enfrente solamente los del mismo portal y bastante lioso efectivamente pero

se quedan a verlas venir con lo cual con esto no me ha convencido gainerakoan iruditzen zait badagoela

que este acuerdo es mejor para la ciudadanía vasca que el de hace un año

que el acuerdo sea más firme en defensa de las decisiones de la ciudadanía vasca que el de hace un año

con un acuerdo que concita un acuerdo político menor que el de hace un año y hoy esto que son verdades irrefutables contrastan con otra pregunta si la ciudadanía vasca no gana nada con el acuerdo de hoy quién gana

para nosotros ha quedado claro que el que gana es el pnv gana blanquear sus pactos con el partido popular

del mismo modo que ha quedado claro que la izquierda vasca no gana nada hoy con este acuerdo

ni mayores cuotas de contenido social eta akordio edo gurekin

con defender que se respete la voluntad democráticamente expresada de la ciudadanía vasca la segunda compromiso por hacer del nuevo estatuto el mejor estatuto para la ciudadanía vasca garantizando que se blindan los derechos sociales que se blinda el empleo la educación la salud pública garantía de ingresos inclusión social igualdad real

un compromiso con promover mayorías amplias plurales y transversales las mayorías que necesita la sociedad vasca

del mismo modo que vamos a denunciar cualquier intento de veto o bloqueo del partido socialista de euskadi o partido popular

modelo catalán nosotros creemos que euskadi tiene un camino propio

nuestro modelo desde el primer momento y no ha cambiado hemos sido firmes en eso

ha sido el de las consultas pactadas bilaterales y negociadas y ahí seguimos es más desde aquí puedo afirmar que ahí seguiremos y si en algún momento llegáis a una conclusión a la misma conclusión pues

donde nos jugamos poco menos que el futuro de la humanidad cada vez que ustedes traen una propuesta a este parlamento y la verdad es que no es así porque la discusión debe de ser un poquito más sencilla a

que la democracia son también reglas que no hay democracia que funcione sin reglas porque las democracias que así se quieren llamar pero no tienen reglas

muy frecuente que acaben en regímenes de pensamiento único porque no hay reglas precisamente porque no se respetan

y luego esa especie de binomio que hacen ustedes automático entre soberanía y progreso social pues permíteme que le diga que es absolutamente falso vienen a decir lo que hace españa es malo no porque lo haga la derecha o la izquierda no porque lo hace españa y si lo haríamos solo los vascos sería estupendo

tenemos miles de ejemplos por desgracia en europa en donde bajo el paraguas de defender la soberanía nacional se están proponiendo y haciendo verdaderas barbaridades

y su terruño pero están haciendo verdaderas barbaridades es decir porque la soberanía vasca fuera plena eso no es ninguna garantía per se de que los servicios sociales sean mejores

en absoluto puede pasar todo lo contrario y al contrario en el estado en función de la ideología

por lo tanto eso no depende del marco territorial sino de la ideología política que lo sustente porque aquí

a pesar de que estén en horas bajas y no es lo mismo que gobiernen unos o que gobiernen otros

o en el otro luego ya sé que usted se ha dedicado aquí a cortejar un poco

a ver si le podía seducir o tratar de llevar el agua a su molino pero en fin luego usted me criticaba el símil que hacía yo

es que a mí me da lo mismo que sea el portal de al lado donde se plantea el asunto el caso es que ambos portales comparten la misma comunidad de vecinos tienen un tejado común

ni levantar las aceras porque afecta a todos los demás portales de la misma comunidad yo vivo en una de ellas y usted seguro que también

de vecinos que tiene reglas que tienen unos estatutos que rige la convivencia usted no puede hacer de su capa un sayo cuando un día se le cruza la vena y dice voy a cambiar las ventanas y ahora derribo el tejado

no se puede sencillamente no se puede porque eso es despreciar al resto de los vecinos que tienen el mismo derecho que usted a opinar sobre lo que se hace en su comunidad

vaya a imponer un veto a nada es que nos oponemos radical y firmemente a que euskadi se deslice por la senda de cataluña

veto o lo que quiera pero estamos en nuestra posición política legítima faltaría más para oponernos con contundencia y con radicalidad

vaya por esa senda de enfrentamiento y de empobrecimiento económico y social por lo tanto señor egibar decía que él no puede decidir cuáles son las proposiciones no de ley que presenta

en todo caso es posicionarse con coherencia en torno a esas proposiciones no de ley yo le pregunto

hoy ustedes van a votar a favor de sin enmienda alguna exige al estado español

cumpla la ley o no la cumpla dónde está la coherencia entre respaldar esto y afirmar lo que hemos afirmado en numerosas ocasiones que se haga lo que se haga deberá de respetar el ordenamiento jurídico

un documento que no cumple la ley modifíquese la ley para que el documento tenga encaje

pero esto yo creo que ya en la adolescencia lo habíamos superado oiga hay unas normas de las que nos dotamos para convivir que respetamos y si no gustan se cambian pero no se cambian porque yo quiero sino se cambian en comunidad de común acuerdo y además donde hay que hacerlo

parece básico y además entrando otra vez en el terreno este de principio de legalidad del principio democrático vamos a ver yo creo que es importante dejar claro una cosa no se puede disociar

es que la democracia emana de un ordenamiento jurídico que permite la convivencia entre diferentes de unas normas de las que nos dotamos

no vale decir oiga mire aquí sumamos tres cuatro hoy circunstancialmente y cambiamos me salto la ley porque yo creo que es así pero es que insisto lo hemos visto en cataluña

en el ancho mundo fundamentalmente en el mundo desarrollado y no

es el respeto y el acatamiento del ordenamiento jurídico y de ley de la que nos hemos dotado para convivir esto es básico lo decía y lo recordaba

el señor pastor y a partir de aquí pues podemos hablar casi de cualquier cosa pero siempre observando

y el señor egibar también ha glosado los avances derivados de la autonomía y es verdad y esa parte la he compartido es decir euskadi ha avanzado en estos cuarenta años como nunca en su historia

de las que nunca habíamos tenido y además hemos experimentado un progreso social y económico inédito en nuestra historia que efectivamente nos ha permitido tener una sanidad pública que es referencia nos permite tener un sistema educativo una policía propia un sistema fiscal es decir un nivel de autonomía prácticamente pleno

en otra fase es decir ya no vale ya hay que seguir alimentando el conflicto y la reivindicación permanente y ahora estamos en la fase nacional lo ha dicho usted en la fase del reconocimiento nacional bueno para empezar nosotros creemos que estamos en otra fase efectivamente pero estamos en una fase de haber qué hacemos con lo que tenemos oiga esta semana se está evaluando pisa

en el sistema educativo qué reformas ha hecho este gobierno con el sistema educativo ninguna

un futuro en el que sigamos manteniendo nuestro nivel de protección social

población envejecida y que además tiene unos retos demográficos

por qué no estamos en esa fase ya de debatir sobre estas cosas que realmente nos hacen ser modernos y nos hacen ser nación

debemos de debatir qué reformas económicas de carácter fiscal hacemos para que por ejemplo no sé sigan yendo jóvenes de esta tierra y sigan teniendo oportunidades aquí es que enarbolando una bandera más grande

o la mayoría de jóvenes que no ven oportunidades en esta tierra y se van

como vamos a conseguir que los jóvenes vean aquí una oportunidad de futuro o de incertidumbre si avanzamos por ese camino y termino ya señora presidenta con una referencia

y ha venido a decir que claro que también se produjo un cambio de legalidad el sistema feudal mire en el año mil setecientos ochenta y nueve

lo que sucede entre otras cosas además de otros acontecimientos es que efectivamente lo que pasa a gobernar la vida de los estados modernos y de los ciudadanos es el imperio de la ley precisamente lo que ustedes quieren hacer saltar hoy vamos hacer un poco de pedagogía porque no podemos aceptar casi cualquier cosa lo que sucede después de la revolución

es que la iglesia el ejército y la nobleza dejan de mandar

en base al principio de legalidad al de observancia de la ley

volver a un sistema feudal el que no sé quién por tener

manda sobre los parlamentos que aprueban las leyes para convivir y esto no puede ser señorías

estamos planteando imposibles yo creo que hay que partir por ejemplo de la resolución aprobada por el parlamento vasco la semana pasada si me quiere escuchar

la resolución de la semana pasada sobre el incumplimiento estatutario treinta y nueve años después se identificaba el problema y es evidente y flagrante el incumplimiento sistemático el que usted

que lo hace emplazando al partido nacionalista vasco al gobierno al lehendakari al respeto a la legalidad cuando menos después de constatado todo eso la parte que les toca desde luego es además de irrespetuosa injusta

sarcástica tanta apelación a quien ha incumplido sistemáticamente una ley orgánica

cuando se me decía el ciento cincuenta y cinco y a ver el partido nacionalista vasco por dónde

sobre los derechos humanos de todas las personas cuando se hablaba y se habla del concepto de

yo creo que también trasladado a lo que es a relación entre los pueblos

es lo que tenemos que abordar de una manera consensuada democrática

convivir desde el respeto y el reconocimiento entre los pueblos y no coexistir

o descoexistir en la subordinación

es tan difícil buscar fórmulas de convivencia que supongan respeto y reconocimiento entre sujetos políticos

ni refugiar en el argumento de la construcción nacional estamos hablando de la construcción social

lander martínez territorio sin personas es paisaje construimos sociedad

construimos una sociedad lo más justa posible sobre las bases del progreso y la justicia social son dos caras de la misma moneda la construcción nacional y la construcción social pero bueno como esa apelación reiterada a que parece que

territorios sin personas es paisaje nos gustará más o menos pero es paisaje son las personas las que constituyen los pueblos

que también desde la configuración del respeto entre los pueblos

convivencia algún vínculo vamos a tener con el estado español es evidente pero si buscamos fórmulas de convivencia será desde el respeto y reconocimiento no desde la subordinación

va a existir un vínculo ahora es desde el reconocimiento y el respeto o es desde la subordinación

ese es el debate y tenemos una oportunidad impresionante para aprovecharla desde luego nosotros vamos a poner nuestra condición y esfuerzo en el empeño de sacar un acuerdo lo más amplio posible y evidentemente estamos de acuerdo

ocho barra dos mil diez un real decreto ley que ha sido el más restrictivo en cuanto a los recortes a trabajadores y trabajadoras públicas y el que ha establecido efectos perennes a día de hoy no ha sido el único de los reales decretos ley que ha aprobado el estado

pero sí ha sido el más restrictivo y de efectos perennes provocó la congelación de las pensiones provocó recortes en la ley de dependencia

y provocó entre otras la reducción de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras públicos vascos de un cinco por ciento hubo más

acabó con las treinta y cinco horas semanales que congeló las oposiciones que provocó la amortización de las plazas de todas las trabajadoras y trabajadoras que se jubilasen

que provocó un recorte adicional de licencias y permisos

de sueldo a aquellas personas que estuvieran de baja médica todos estos reales decretos ley todos ellos ligados a la aprobación de los presupuestos generales del estado todos y cada uno de ellos presupuestos generales del estado igual a recortes

la atribución al estado de la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios

esta atribución de la competencia exclusiva fue utilizada como excusa está siendo utilizada como excusa para regular todo los permisos el horario las bajas médicas los sueldos las pagas extras todo se regula y este espíritu es el que está

que está tratando de poner el gobierno contra los presupuestos de euskadi de dos mil dieciocho cuál ha sido cuál fue la respuesta del gobierno vasco en cada momento la primera aplicar estos recortes sin cuestionarlos sin cuestionarlos y la segunda

incluso nuevos recortes no contemplados en su día por el estado como por ejemplo reducir el cinco por ciento el salario a los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas vascas algo que no contemplaba la normativa estatal y que tuvo que ser el propio tribunal constitucional el que tumbara con una sentencia en dos mil quince

edo euskal langile publikoen alde el papel del pnv en todo este proceso ha sido el de tener una clara doble moral por un lado han denunciado fuerte y alto la intromisión competencial del gobierno

y sin embargo han aceptado han acatado los recortes impuestos

aplicar han demostrado que no es su prioridad trabajar contra los recortes a los trabajadores y trabajadoras vascas que no es su agenda

el recuperar las treinta y cinco horas para el profesorado vasco que no es su agenda el sueldo de jueces fiscales y el personal de justicia

la utilización por parte de rajoy de instrumentos legales para limitar el autogobierno y de callar sin embargo ante los recortes impuestos con estas mismas herramientas legales ya no tiene lugar se acabó el momento de las medias tintas se acabó el jugar con dobles barajas no solo el pnv

si están con el partido popular y con los recortes ligados a los presupuestos generales del estado o están con los trabajadores y trabajadoras públicas vascas
ustedes deciden eskerrik asko becerra jauna

señores consejeros hoy el grupo elkarrekin podemos nos trae un debate sobre yo creo que la mayor bofetada que pudieron recibir los funcionarios los trabajadores públicos de todo españa gracias a ese real decreto ley ocho barra dos mil diez del veinte de mayo funesta que ponía una guinda a unas políticas funestas que habían llevado al estado a la ruina más absoluta a la destrucción de puestos de trabajo al quebranto de las economías familiares a la destrucción del tejido empresarial en suma a la ruina total del país y mayor endeudamiento que habíamos recibido nunca generándonos encima unas primas de riesgo tan elevadísimas que

continuar comprando deuda era prácticamente imposible o hacía que esa deuda era imposible de devolver por los intereses que se tenían que pagar la peor medida que ha tomado yo creo que nunca un gobierno de cara a los funcionarios públicos ese planteamiento señor becerra nosotros lo compartimos igual que hasta ahora

una medida nefasta una medida que fue redactada no para paliar una situación temporal es una medida que vino para quedarse y usted lo ha significado muy bien señor becerra porque no fue una medida que congelaba las pensiones momentáneamente o por un periodo de tiempo no lo hacía indefinidamente no fue una medida que

durante ese año no lo hacía para siempre no fue una medida que retiraba ayudas a la natalidad para ese año no las retiraba para siempre fue una medida que llegaba tarde y mal porque se había querido cerrar los ojos ante la situación de crisis que vivía el país

de españa era una situación de crisis mundial una crisis financiera que llevaba años mermando la economía de todos los estados de nuestro entorno pero que aquí en todo momento se había negado y todas las políticas que se emprendían eran precisamente en sentido contrario para hacer más grande

este real decreto ley a unos presupuestos generales del estado y eso yo ya no lo comparto no lo comparto porque el real decreto ley lo que hacía precisamente era modificar los presupuestos generales del estado que era el instrumento que tenía el gobierno

y que precisamente iban en sentido contrario y pocos meses después de aprobarlo tuvo que tomar estas medidas para tratar de paliar el agujero por cierto

no sirvió absolutamente de nada porque el agujero siguió creciendo no era cuestión solamente de reducir el gasto sino que lo que había que hacer era lógicamente incentivar la actividad económica que al final es lo que

su función pero si el análisis de la desastrosa medida señor becerra sí lo compartimos lo que no podemos compartir es la receta que usted nos propone hoy ni siquiera la que eh bildu a través de la señora ubera nos ha puesto encima de la mesa con su enmienda no lo compartimos porque simplemente derogar ese real decreto ley no devolvería en absoluto el poder adquisitivo perdido a los funcionarios a todos los trabajadores del sector público

sino en general a todos los que afectó en aquel momento aproximadamente el trece por ciento de la población activa que le insistimos nos retrajo ese cinco por ciento durante

años siguientes posteriores a la toma de aquella medida eso no les iba a devolver ese dinero que dejaron de percibir

no iba a salvar ese problema hay que ir a otras soluciones hay que ir a otras vías y por eso señor becerra desde el grupo popular no podemos apoyar la iniciativa que nos ha traído encima de la mesa a debatir hoy y menos todavía podemos defender la postura apoyar o aprobar la postura que nos propone eh bildu que obliga al gobierno a saltarse la ley unilateralmente calcular el dinero que dejaron de percibir todos esos trabajadores públicos e inmediatamente

y devolvérselo a los trabajadores públicos dos consideraciones me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho que ellos llevan ese debate donde están ellos en la mesa general yo pensaba

quienes están representados son el gobierno y los representantes de los trabajadores no los representantes de los ciudadanos yo no sabía y espero que si son los representantes de los ciudadanos al grupo popular nos inviten a esas reuniones y a esas negociaciones porque ella ha dicho que su grupo está allí no sé a través de quién o representando qué intereses yo pensaba que en la mesa

no de los representantes de los ciudadanos y por eso nosotros no asistimos nunca he intentado hacer un cálculo desde el escaño y no soy muy bueno yo en estas cosas pero más o menos creo recordar que el capítulo primero de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para este año era algo más de los dos mil millónes de euros un cinco por ciento calculo yo que serán cien millónes de euros si nos retrotraemos a que esto empezó a tener efecto en el dos mil diez han pasado nueve ejercicios por lo tanto lo que eh bildu les está pidiendo es que pongan este año novecientos millónes de euros y se lo paguen directamente a los trabajadores públicos que han dejado de percibir ese dinero eso

la legalidad es una barbaridad porque está pidiendo un imposible no creo que al gobierno le sobren novecientos millónes de euros

para ejecutar este presupuesto es absolutamente ruin esa postura de venir aquí a proteger los derechos de los trabajadores y pedir cosas que son ilegales y cosas que no se pueden llevar a cabo porque materialmente son imposibles por eso

no vamos a apoyar tampoco la enmienda que nos han planteado yo les propongo otro camino al grupo popular sí que le preocupan los intereses

si le preocupan los intereses y la pérdida de poder adquisitivo que los gobiernos socialistas

a los trabajadores públicos y por eso se ha firmado un acuerdo

y los representantes sindicales de todos los trabajadores y ese acuerdo prevé una serie de incrementos que en tres años supondrían un incremento de un ocho coma ocho de la masa salarial de los trabajadores públicos es una medida efectiva para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos

por el uno coma setenta y cinco por ciento previsto en los presupuestos generales del estado que se están debatiendo en este momento en el órgano competente que es el congreso de los diputados yo les animo a todos los grupos a que apoyen la tramitación de los presupuestos y con eso conseguiremos recuperar en parte el poder adquisitivo que los trabajadores públicos perdieron después de esa

medida tan nefasta y que tenemos todos en el recuerdo afortunadamente

al estado no consiguieron llevarlo a la quiebra

no de ese cinco por ciento fatídico de una rebaja de las pensiones no de una congelación indefinida como hicieron en aquel momento tiempo al tiempo la recuperación económica va para adelante ya no se pierden puestos de trabajo

aquí estamos hoy debatiendo de un cinco por ciento de pérdida de la masa salarial de los trabajadores públicos

perdieron no de cinco por ciento el cien por ciento de su retribuciones

aquellas políticas erróneas aquellas decisiones tan nefastas llevaron a la ruina de este país trabajemos en sentido contrario apoyen las medidas necesarias y

si se cumplen las medidas que ya ha pactado la administración con los sindicatos no en la mesa general sino en las reuniones que tienen a cabo en el ministerio de administraciones públicas muchas gracias

de dos mil diecisiete el grupo parlamentario de elkarrekin podemos registra en la cámara del parlamento vasco una proposición no de ley para la derogación del real decreto ocho barra dos mil diez según su propia justificación dice que se les antoja la solución más rápida y sencilla para revertir los recortes aplicados a la función pública una medida que justifican debe a cometerse en el ámbito estatal

para hacer una solución tan sencilla y tan rápida han tardado ustedes

en traerlas al debate de esta cámara porque en el congreso ni están ni se les espera con esta medida este parlamento ya ha tenido la oportunidad a instancia de otros grupos políticos de debatir sobre la recuperación de las condiciones laborales del funcionariado la más reciente fue en noviembre del año dos mil diecisiete y desde esta tribuna los socialistas lo que manifestábamos es que creíamos compartir con el resto de grupos políticos que el objetivo a perseguir era tener una administración eficaz

de calidad porque para nosotros la prestación de unos servicios de calidad es reconocer derechos de ciudadanía es una expresión para ejercer solidaridad igualdad y cohesión social

el único que existió y no recordamos aquello que se conoció como los viernes de dolor

dos mil dieciséis que algunos no quieren ni mencionar y hoy exclusivamente hablamos del real decreto ocho barra dos mil diez bueno yo no les voy a empezar a contar

el tema de en qué situación económica se encontraba no españa

incluso a nivel internacional estados unidos se encontraba también allí empezó la recesión tuvimos políticas expansivas todos los países aplicaron políticas expansivas y paquetes de estímulos fiscales que consiguieron

los efectos negativos de la recesión pero que tuvo una consecuencia y fue el incremento del déficit las cifras de endeudamiento

abultadas y eso mutó por una actuación de los mercados de capital en un problema de solvencia lo que desencadenó

y con las circunstancias de otros países que también todos conocemos y yo no pienso mencionar en la aprobación de un mecanismo que exigió a todos los países del arco europeo

acelerar las medidas de consolidación fiscal y de reducción del déficit en aquel contexto y no en otro se tuvo que aplicar el real decreto ley ocho barra dos mil diez y sí se adoptaron medidas

sin lugar a dudas que no fueron deseadas por nadie ni tan siquiera por los gobiernos que tuvieron

pero que eran necesarias en un contexto de crisis en el que se tuvieron que adoptar y es verdad se han exigido sacrificios y esfuerzos pero no solo a los funcionarios

y ahora bien usted entenderá señor becerra que yo no pueda compartir con usted esa manifestación que me hace en su justificación y que además ha puesto aquí de manifiesto de que el gabinete

aplicando los recortes dice en su justificación incluso con un rigor superior

nada más alejado de la realidad porque lo que hizo el gobierno socialista es aplicar una tabla propia del ajuste que era diferente a la que aplicaba el ejecutivo central

no se cumplía un principio de equidad ni de progresividad y había algunos tramos que con renta inferior tenían un recorte superior

fue desde el cero coma cincuenta y seis por ciento hasta el ocho por ciento que se aplicó a los miembros del gobierno por tanto se

de tal forma y esos datos se pueden recoger la reducción media se situó en torno al dos coma ochenta y seis por ciento por tanto los datos

eso que usted intenta decir en su justificación ahora bien voy a compartir

en esa situación estamos en un proceso de recuperación económica es un proceso y una situación en la que se tienen que producir

del sector privado puedan recuperar las condiciones laborales que entonces tenían es una reflexión que tampoco es ajena en esta tribuna porque si usted recuerda ya como hace un año en mayo del dos mil diecisiete

para exigir que esos datos macroeconómicos que estaban siendo positivos se trasladaran ya a la economía real a través de la negociación colectiva entre patronales y sindicatos para que hubiera una subida generalizada de los salarios de los y las trabajadoras

suficiente y no quisieron estar con nosotros y luego también en el debate que hicimos en noviembre también salió aprobada por este parlamento una proposición entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista que establecía también que es a través de la negociación colectiva en la mesa

las propuestas de incremento salarial que nosotros compartimos deben de realizarse y a usted no se le escapará que desde el año dos mil dieciséis se han ido alcanzando acuerdos para ir recuperando condiciones laborales que se fueron perdiendo las de jornadas de días adicionales de permiso eso no lo digo yo nos lo dijeron los sindicatos aquí en comparecencia y yo ya lo recordé también en esta tribuna en el mes de noviembre

de incrementos retributivos después de cinco años de congelación cinco señor ruiz de arbulo cinco años cinco

una actuación permanente cuando ustedes en el dos mil doce podían haber adoptado la decisión

de haber revertido ese recorte si tanto estaban ustedes en contra de él y haber aplicado los siguientes años los incrementos retributivos mínimos del ipc que tan siquiera le dieron a las pensiones públicas entonces hipocresía y cinismo el justo

y tienes que cumplir determinadas condiciones que hay decisiones que te pueden gustar o no pero que a veces tienes que adoptar

en otro porque usted me comenta el esfuerzo que se les hizo pedir a los funcionarios públicos pero usted no se acuerda el que se les exigió a los trabajadores cuando se les redujo la cobertura del desempleo o cuando se hizo la reforma laboral

a usted esos no les parece los más vulnerables de la crisis le debió parecer solamente el recorte de la función pública

tendría para recordarle los viernes de dolor creo que recordar que en un periodo de caso tres años o sea que en fin lo dijimos entonces señor becerra y se lo vamos a decir ahora nosotros creemos que la dirección en la que se debe

en cuanto a la actuación de la administración es ir adoptando medidas dentro de esa negociación colectiva con los sindicatos que representan

las condiciones laborales que en su momento tuvieron que ser remitidas no solo aquí

del estado por eso tampoco compartimos la exposición que aquí ha realizado la señora ubera

lo desconoce que la derogación o no de este real decreto ley

para la recuperación de las condiciones laborales de los funcionarios sino que es a través de otros instrumentos y se lo ha querido lanzar aquí el señor

decirle y ligarle y decirlo que esto está ligado a las leyes de presupuestos que es donde

algún otro partido algún otro grupo parlamentario que interviene aquí pero que luego legisla en el estado nos diera ese margen para poder hacer aquí otras cuestiones que usted considera que son

bofetadas pues no nos dé bofetadas y permítanos que aquí se negocie

salarial de los funcionarios permítanos el tema de ofertas públicas de empleo para tasas de reposición y mejora de la interinidad

en esa ley de presupuestos que ustedes han presentado y que de momento no lo recoge lo que ha hecho es iniciar un proceso para un recurso de inconstitucionalidad ahí sería donde podríamos creer que ustedes tienen realmente un interés por la función pública pero desde luego desde esta tribuna

convencer ese es el motivo por el que el grupo socialista por la falta de efectos prácticos que tiene

abstendremos a la misma eskerrik asko

públicos del gobierno vasco desde el dos mil diez este es el título de la iniciativa que elkarrekin podemos nos ha traído para su debate sin embargo si

como causante de esos recortes y como solución para los mismos

plenamente superada y solicitan su derogación su derogación al congreso de los diputados en concreto

por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público nuestra posición ha sido siempre clara desde el inicio mostramos nuestro rechazo a este real decreto ley lo hicimos en el dos mil diez y lo volvemos a hacer hoy aquí ocho años

lo hicimos en el congreso de los diputados y también lo hicimos en este parlamento lo hicimos incluso antes de que podemos existiera es verdad que en el dos mil diez había que adoptar medidas se estaba en una situación de crisis había que realizar ajustes

ni el fondo de aquellas medidas consideramos que fueron injustas y además

nuestro modelo propio nuestro autogobierno quedó afectado desde el punto de vista presupuestario financiero

el marco vasco de relaciones laborales ese contenido el contenido de ese real decreto se fue materializando se materializó en diferentes leyes presupuestarias y fue superado por otras normas en concreto

también cuando el partido popular llegó al gobierno en madrid no solo mantuvo

intensificó y cabe señalar los reales decretos ley veinte barra dos mil once y

por lo tanto el real decreto ley ocho barra dos mil diez fue únicamente un eslabón en la cadena y por tanto cuando ustedes elkarrekin podemos dicen literal que lo ha nombrado una portavoz anterior

ni es la más sencilla ni tiene ningún efecto jurídico como sabe su iniciativa no tiene ninguna virtualidad jurídica por lo tanto entendemos que no tiene mucho sentido el único sentido traerlo aquí para hacer otro discurso desde luego no para mejorar las condiciones de la función pública vasca y en cuanto a la

y me remito a aquella exposición en la que como también ha nombrado usted señora ubera y le dijo

un dirigente de su partido por lo tanto no nos va ahí hay un marco legal y presupuestario

unos por obligación y otros por convicción no lo sé nosotros desde luego estamos en la casilla de la obligación no sé ustedes en cuál estarán si están en la de la convicción o en la de la obligación pero afortunadamente

la situación en la función pública vasca ha mejorado desde dos mil diez

es mejorable por supuesto pero ha mejorado y no ha mejorado desde luego gracias a iniciativas

gracias a medidas adoptadas por este gobierno a

adoptadas en el marco de la negociación colectiva y siempre teniendo en cuenta los límites por un lado las dificultades que ha generado la crisis económica

cada vez es más amplia y aquí todos unos dicen que es una excusa pero aquí como dice el señor montoro todos acaban cumpliendo o por convicción o por obligación y ustedes también

y entre esas mejoras destaca el presupuesto que aprobamos en este parlamento para dos mil dieciocho que por cierto ustedes no aprobaron con lo cual poco contribuyeron a las mejoras de las condiciones laborales

público vasco no han contribuido y ese presupuesto contenía

muchas cosas positivas para la ciudadanía vasca y en concreto también para la función pública como la subida salarial se reactivaban las aportaciones a itzarri

de la administración la consolidación y la creación de empleo el relevo generacional la igualdad y además hasta el momento ya ha habido otras mejoras como son las de incremento de las plantillas en la rpt

y todas estas medidas a pesar de las constantes injerencias del estado en el marco competencial que ha establecido el estatuto de gernika en este sentido compartimos

señora ubera esa parte de su exposición y específicamente en la capacidad de auto organización y el régimen de personal y el último ejemplo de esta injerencia o esta intervención

contra nuestros presupuestos y ustedes dicen que los criticamos o que nos sorprendemos ahora pues claro que lo cuestionamos porque cuestiona nuestros presupuestos

una parte esencial de nuestro autogobierno los presupuestos aprobados por este parlamento guk behintzat gure aurrekontuak defendatuko ditugu

euskadirentzat ona izango delako izango da orain arte bezala lo cierto es que la iniciativa no tiene el objetivo

quiere enmarcar la agenda política del pnv y en concreto

fíjese qué urgente y relevante era para usted esta iniciativa la función pública que la había tenido un año en el cajón

de iniciativas y preguntan insistentemente qué dónde se van a posicionar el pnv qué va a hacer el pnv con los presupuestos generales del estado para dos mil dieciocho pues miren ya les dijimos la semana pasada y se les ha dicho en repetidas ocasiones que este no es el foro y desde luego no es el objeto

es que tenemos aquí unos presupuestos aprobados que contienen mejoras para la ciudadanía vasca y en concreto para la función pública vasca y que ustedes por cierto como les he dicho no aprobaron y también y llegados a este punto la verdad que me crea confusión no sé realmente qué vamos a someter a votación no sé si vamos a someter a votación

o vamos a someter a votación las iniciativas que ustedes traían

y si realmente sometemos a votación si finalmente sometemos a votación la iniciativa que traían bueno pues les adelanto que nos abstendremos en la suya y votaremos en contra de la de eh bildu por los argumentos expuestos

señor ruiz de arbulo lo dice usted que este real decreto ley fue nefasto

a que apoyen su derogación en eso coincidimos totalmente lo que no comparto con usted es que diga que la derogación no es efectiva fíjese en la disposición adicional segunda decía

digo de este real decreto la suspensión del acuerdo gobierno sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social dos mil diez dos mil doce firmado el veinticinco de septiembre de dos mil nueve

es decir si dejásemos fuera de efecto esto

el gobierno actual ha firmado otro acuerdo en dos mil dieciocho

la palabra de montoro no vale nada y la palabra del gobierno de españa no vale nada porque si no se aprueban en los presupuestos generales del estado de dos mil dieciocho ese acuerdo es papel mojado

porque mientras se legisle a través de reales decretos ley que condicionan a todas las administraciones pues es lo que tendremos

la señora castelo ha dicho que el gabinete de patxi lópez

hay una sentencia del tribunal constitucional de dos mil quince que dejó claro que el gabinete

había impuesto recortes a los empleados de las empresas públicas

eso no era correcto pero bueno en cualquier caso usted ha dado la clave porque le ha dicho al señor ruiz de arbulo permítanos

del gobierno que gobierna en españa permítanos tener una ope permítanos mejores

si es que la realidad es que a día de hoy a través de los reales decretos ley y este fue el primero de ellos se ha limitado la capacidad de todas las administraciones

se ha limitado porque aunque exista la competencia exclusiva del estado estuvo veinte años sin cumplirse

solamente se activó cuando interesaba y ahora no se quiere renunciar a eso ha dicho la señora larrauri

es posiblemente el real decreto ley que mantiene sus efectos perenes y eso el señor ruiz de arbulo lo ha confirmado el recorte del cinco por ciento se mantiene a día de hoy no se puede recuperar la capacidad adquisitiva porque se mantiene ese recorte derogarlo sí tiene virtualidad jurídica y además tiene virtualidad política también

de defender aquí nuestra capacidad de autogobierno

impuesto desde el estado en cuando a recortes y eso es lo que ustedes no han hecho claro que

nos gustaría condicionar la agenda del pnv pero no tenemos capacidad solo ustedes pueden cambiarla y en la agenda del pnv nunca ha estado

a las negociaciones de los presupuestos generales del estado diciendo no aprobaremos no apoyaremos estos presupuestos generales del estado mientras ustedes mantengan este tipo de reales decretos ley

su agenda ha sido otra diferente ustedes sabrán cuál

dice usted no sabemos qué va a pasar con los presupuestos generales del estado ortuzar ayer dijo textualmente tenemos una semana y vamos a hacer

es un eufemismo la estabilidad es mantener los recortes mantener las condiciones injustas

claro que saben ustedes qué va a pasar lo que va a pasar es que una vez más

que decidir qué apoyar o qué no apoyar van a ir a favor de a apoyar unos presupuestos que siempre conllevan recortes
y van a dejar de lado una vez más a los trabajadores y trabajadoras vascas y a sus condiciones laborales eskerrik asko becerra jauna

ruiz de arbulo jaunak aipatzen du guk

gracias señora presidenta yo pensaba que habíamos subido hablar aquí del real decreto ley ocho barra dos mil diez pero ya veo que

yo no sé quién quiere poner en evidencia si se votan o no se votan los presupuestos generales del estado o qué luchas políticas internas quedan por detrás

señora ubera usted me dice que yo no le acuso de pretender saltarse la ley y efectivamente el punto segundo de su enmienda lo que dice es que se suspenda ese recorte

para hacer eso es necesario un marco legal que en este momento no existe hacerlo sin marco legal y usted no habla de ningún tipo de proyecto de ley de ninguna reforma legal

hacer eso supondría una ilegalidad y no creo que el señor erkoreka aquí presente

de tener que acabar en los tribunales dando explicaciones por saltarse las normas en cuestiones tan claras tan básicas y que nadie ha recurrido desde el dos mil diez hasta hoy porque nadie pone en duda que eso es normativa básica del estado y si no estoy seguro de que quienes no estuvieran de acuerdo habrían acudido a los tribunales bien sean los gobiernos afectados todos los del país o bien sean todos los

y estoy seguro de que jueces y tribunales si hubiera sido ilegal la medida afectados también por ese cinco por ciento de recorte hubieran dado la razón a aquellos que demandaban la devolución de su dinero que es una ley que está aprobada es una decisión es una decisión inútil porque las decisiones pueden ser malas y dolorosas pero es que encima fue completamente inútil porque no solucionó ningún problema porque llegó muy tarde después de años

de decir que no ocurría nada de decir que no había ningún tipo de crisis de decir que las cosas iban absolutamente bien y fenomenal cuando ocultaban la realidad a todos los ciudadanos hubo que dar este tortazo ustedes dejaron el gobierno y hubo que practicar muchos más ajustes por supuesto que sí

ajustes posteriores que sí eran revertibles porque cuando se retiró la paga extra a todos los trabajadores públicos en el mismo real decreto ley se explicaba en qué condiciones se podía devolver y cuándo se podía devolver y se ha devuelto

estos no estos vinieron para quedarse porque se hizo para quedarse porque eran fruto del desgobierno que teníamos en el país en aquel momento y yo les insisto voy a votar en contra no me voy a abstener porque no sé lo que estoy votando señora larrauri si los presupuestos de madrid si la derogación que no sirve de nada mire

de nada jurídicamente es un debate político pero no sirve absolutamente para nada no tendría ningún efecto ninguno sobre las percepciones salariales de los trabajadores públicos por lo tanto nosotros no estamos a favor

pero ya le he explicado cuál es el camino yo no vengo a decirle que lo suyo no sirve de nada yo simplemente vengo a exponerle que ya hay soluciones

que ya hay un acuerdo entre el ministerio de administraciones públicas y los representantes de todos los funcionarios públicos del estado que está en marcha lógicamente usted me dice que no cree en la palabra del gobierno de españa y que eso es papel mojado y que mientras no haya presupuestos no se podrá poner en marcha lógico cualquier incremento salarial de los trabajadores públicos

no se podrá poner en marcha pero es que todas las decisiones económicas del país se verán paralizadas y todos los acuerdos quedarán en el aire si no hay presupuestos ahora si ustedes creen que el verdadero interés de los ciudadanos es

y no podremos poner en marcha ese acuerdo que seguramente es mejorable

pero oiga después de los tortazos que se han llevado los trabajadores públicos

volver a recuperar prácticamente un nueve por ciento con ese incremento salarial su poder adquisitivo yo creo que no es una mala medida para empezar ahora

sí se puede porque gracias a determinadas medidas y a determinados ajustes que se tomaron en su momento la economía crece se genera empleo hay actividad económica por lo tanto hay impuestos recauda dinero el estado y este tipo de políticas públicas se pueden poner en marcha con los instrumentos que son los realmente necesarios y los que la ley nos establece que son

si no hay presupuestos yo apostaría por que sí que habrá un incremento para este año en las retribuciones de los trabajadores

llegar en tres años al ocho coma ocho por ciento porque sin presupuestos no seguiremos reactivando la economía que al final y a la postre es lo que permite

no afectó a las empresas del sector público vasco solamente afectó a las empresas que tenían la consideración de sociedad anónima dependientes del ente público de e i te be y sino pregúnteselo usted a los trabajadores del ente público y a los trabajadores de las empresas y entonces se aclarará de esa cuestión dice que no condicionan la agenda del estado porque no quieren

porque tuvieron ustedes una oportunidad de oro para no investir presidente al señor mariano rajoy y haber investido presidente al señor

o no condicionan porque ustedes anteponen otras intenciones y la verdad es que a nosotros nos preocupan todos los funcionarios públicos no solamente los de aquí

toda la función pública y creemos que la senda o el camino en el que hay que estar es en el de la negociación con los sindicatos para ir

un escenario de recuperación de condiciones laborales que por cierto es lo que su grupo ha propuesto en el congreso en el mes de marzo del dos mil dieciocho no se han ido a una derogación del real decreto ley han ido a una serie de medidas para la recuperación de condiciones laborales y habla de cosas

y hablan de las tasas de reposición hablan de las ope extraordinarias hablan de que se abra la posibilidad de negociar

en todas las administraciones públicas hablan de los complementos por jubilación de eso es de lo que hablan dónde donde lo tienen que hablar que es en el congreso de los diputados y no en esta tribuna por eso le decíamos que igual

a otras cuestiones y cuando eh bildu me comenta la señora

qué convenio se tiene que aplicar pues se tiene que aplicar el convenio colectivo de aquí

hace falta que esos convenios se firmen y que demos contenido a ese acuerdo de estructura que en enero de dos mil diecisiete

del ataque que se quiere producir a través de los tribunales ahí es donde tenemos también que focalizar lo nuestro porque el resto decir que disolvamos el parlamento vasco en un tema

en plan irónico me lo dice usted no como tienen que venir aquí a vender su libro sea cual sea el tema que saquemos hombre me lo voy a tomar con que eso de disolver el parlamento lo ha dicho usted en un tono ciertamente

y cuando me dicen ustedes el señor ruiz de arbulo que la decisión fue inútil que llegó tarde llegar tarde no sé si llegaría tarde lo que fue es hay un refrán que dice otros vendrán que bueno te harán

lo que nos pasó porque ustedes lo que hicieron posteriormente fue adelgazar la administración pública sin ningún tipo de rubor sin importarles si eso afectaba a la sanidad si eso afectaba a la educación si eso afectaba a la dependencia les importó

que supuestamente son reversibles pero no los revierten

las prestaciones por desempleo las bajaron del sesenta por ciento al cincuenta por ciento para incentivar a los desempleados esos que se van al paro porque les da la gana a que tuviesen una

que crean empleo pues bueno aun a pesar de eso siguen ustedes con la rebaja de la prestación por desempleo fogasa paga menos cantidades cuando un trabajador se ve en la calle y su empresa se declara

pueden hacerlo no pagan ustedes el ipc de las pensiones la situación lo permite ustedes pueden hacerlo el copago farmacéutico eran otros tiempos han cambiado ustedes pueden revertirlo

o no dar vigencia a esos convenios colectivos que regulaban las condiciones de los trabajadores unas condiciones de dignidad eso

por tanto no me venga usted aquí a hablarme de cuestiones absolutamente baladís no les importa ni la calidad ni le importa los funcionarios ni le importa la sociedad pero ahora

seguramente a ustedes también les pongan de patitas en la calle eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

en cuanto a su enmienda lo que he dicho es que ese mismo debate lo tuvimos exactamente igual

a lo que en aquel momento dijimos y por otro lado dice

con responsabilidad hasta el momento su responsabilidad se ha ceñido a decir al gobierno hágalo

la proposición le repito que la proposición inicial ha quedado totalmente desvirtuada ustedes no han venido aquí a hablar

para nada la mejora de las condiciones laborales de la función pública vasca han venido únicamente a intentar marcar la agenda o el ejercicio de la acción política del partido nacionalista vasco y le repetimos que

derogación que plantea usted de este real decreto ley no tiene ningún sentido porque evidentemente ya se ha dicho que ha quedado totalmente superada pero no ha quedado superada gracias a iniciativas

de las que presentan ustedes ha quedado mejorada gracias a las mejoras y a las decisiones

colectiva a las normas que aprueba el gobierno del señor urkullu y dicen ustedes el anuncio de recurso otra vez el anuncio del recurso que un ataque pero yo

claro que les cuestionamos pero es que yo no sé por qué a ustedes les preocupa no sé por qué les preocupa el recurso

esos presupuestos ahora les preocupan ahora los dan por válidos ahora se han dado cuenta que eran buenos para la ciudadanía vasca y por eso les da miedo ese recurso ahora se dan cuenta que eran buenos para la función pública vasca llegan un poco tarde en cualquier caso incurren en muchas incoherencias

aclararlas y por otro lado traen aquí iniciativas que desde luego siempre con otros fines cada semana cogen de rehén a un colectivo

los colectivos que van cogiendo ustedes la semana pasada fueron los pensionistas hoy ha tocado la función pública no sé la semana que viene con qué colectivo nos sorprenderán

no sé estamos dispuestos aquí a sorpresas

siempre lo hacen con un interés partidista y entendemos que así ustedes están desprestigiando nuestras instituciones y qué va a hacer la pregunta del millón qué va a hacer lo único que les interesa qué

que no es el objeto de la iniciativa y que además sean pacientes que se sabrá se sabrá en unos pocos días en cualquier caso

con el partido nacionalista vasco y deberían fijarse más en ustedes en vosotros

diputados y diputadas no estén mirando todo el rato a lo que hace el partido nacionalista vasco y en cualquier caso lo que

si el partido nacionalista vasco adopta algún acuerdo con el gobierno de españa o con cualquier otra institución será porque es

como lo ha sido hasta ahora y al partido popular propone que la única solución la única vía para la mejora es la aprobación de los presupuestos generales del estado yo tengo la vía se adoptó un acuerdo el nueve de marzo presupuestos vía madrid claro

en las negociaciones en materia de función pública

y ha hecho un anuncio de recurso no sé para qué quieren otros presupuestos para recurrirlos de nuevo para no

los compromisos recogidos en él la verdad que no sé para qué necesitamos otros presupuestos en cualquier caso el futuro está por escribir como dijo el otro día

con los mismos y las mismas de siempre con la ciudadanía vasca con los trabajadores públicos y privados con los pensionistas

de siempre con los mismos y las mismas de siempre con los que estábamos antes de que estuvieran ustedes y con los que estaremos si ustedes algún día no están no se preocupen eskerrik asko eskerrik asko

señora presidenta egun on guztioi la equidistancia el empate infinito la equiparación de víctimas y sufrimientos

la construcción del relato todo ello está detrás de muchas de las actuaciones

en ese intento de señalar violencias en los dos bandos

y se acaba poniendo en solfa al estado de derecho pero nada parece importar no parece importar llevarse por delante los instrumentos del estado de derecho a las fuerzas y cuerpos de seguridad no parece importar llevarse por delante

el compromiso de la ertzaintza y del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad en defensa de los derechos y libertades no parece importar

una trayectoria de defensa y lucha contra el terrorismo no parece importar nada cuando de lo que se trata es de contentar a un determinado espectro político que por cierto todavía no ha condenado el terrorismo y todo ello sin que los responsables políticos de la ertzaintza muevan un dedo en su defensa

viene de atrás comienza la secretaría de paz y convivencia en esta labor de desprestigio de la ertzaintza

y convivencia y dedica un capítulo específico a la necesidad de renovar y reforzar el compromiso con los derechos democráticos que debe de tener

cuestionamiento de la profesionalidad y el compromiso de la ertzaintza con los derechos humanos supone una falta de sensibilidad al atentar contra la dignidad y el prestigio de nuestra policía al poner en entredicho

siempre ha tenido los propios agentes lo sintieron como un intento de dar lecciones de ética o de moral cuando estas nunca les han faltado continuando con esa labor de desprestigio de equiparaciones incomprensibles

en los denominados retratos municipales un listado promovido por el gobierno vasco para reconocer a víctimas del terrorismo y otras de víctimas de violencia y motivación política siempre hemos dicho que lo sucedido

que debe investigarse como se está haciendo en sede judicial siempre hemos dicho

debieran depurarse las responsabilidades que en su caso pudieran derivarse siempre hemos compartido el sufrimiento siempre hemos considerado ser sensibles con el sufrimiento de la misma pero desde luego no es aceptable en nuestra opinión bajo ningún punto de vista que se compare con una banda terrorista no es posible que sean los propios responsables políticos los que tienen que defender

los que lejos de ser contundentes y posicionarse claramente en defensa de la misma criminalicen al conjunto de la institución hemos hablado de sensibilidad pues bien también hemos de decir que esa sensibilidad ha faltado en el gobierno vasco cuando se ha permitido concentraciones a favor de terroristas en el mismo lugar en el que se ha asesinado a un agente como sucedió a los pies del guggenheim

se le hizo en ese mismo lugar y la última afrenta viene de la mano del informe sobre tortura entre mil novecientos sesenta y dos mil catorce del instituto vasco de criminología de la upv en dicho informe se recogen

en el informe se viene a elaborar unas sentencias extra judiciales

probablemente podemos estar de acuerdo en que debiera de haber más

más condenas de resoluciones judiciales por torturas pero desde luego lo que no se puede hacer es sustituir las investigaciones y las sentencias judiciales por un encargo de la secretaria de paz y convivencia hay que señalar como dice el informe que solo ha habido veinte casos de condenas por torturas

les voy a enseñar una foto una foto en la que se pretendió quemar vivos a unos

les voy a enseñar otra no se ve muy bien porque corresponde a un video que se gravó mientras unos energúmenos

de bilbao simplemente por eso por ser ertzaina y yo les pregunto esto no es tortura señorías quienes torturaron en este país no fueron

fue eta fueron los chicos de la gasolina como algunos les llamaban y queremos dejar bien claro una cosa

bajo ningún pretexto nunca en el grupo popular condenamos y rechazamos cualquier práctica de tortura o maltrato queremos dejar bien claro

o con el maltrato o con cualquier violación de derechos humanos tolerancia cero las torturas deben denunciarse en sede judicial

investigarse y debe caer todo el peso de la ley sobre aquellos que incurran en prácticas de torturas o malos tratos porque en democracia

de la ley la aplicación de la ley y cuando se cometen vulneraciones de derechos humanos deben perseguirse y castigarse y más aún si se trata de autoridades públicas

que nosotros condenamos sin ambages de manera clara y rotunda a aquellos

de la misma manera clara y rotunda que todos los grupos en esta cámara condenamos

que todos rechazamos exigimos su denuncia

de esa misma manera clara y rotunda yo le quiero hacer una serie de preguntas

en esta cámara condenamos de la misma manera clara rotunda y sin paliativos a eta todos condenamos a los chicos de la gasolina todos condenamos de la misma manera clara y rotunda la paliza que se dio a ander susaeta solo por ser ertzaina todos condenamos

el intento de quemar vivos a unos agentes por cometer el delito de defender los derechos y libertades de todos los vascos de todos nosotros todos en esta cámara condenamos rechazamos exigimos denunciar ante los tribunales los crímenes de eta todos en esta cámara condenamos el régimen de tortura al que eta sometió a nuestra sociedad durante años

han sido asesinados han vivido acosados han tenido que mirar debajo de sus vehículos cambiar sus rutas ocultar su profesión muchos no han podido vivir en sus pueblos eso no es tortura

de treinta años y después de todo esto después de toda esta a la que se han visto sometidos tienen que ver cómo se presenta en esta cámara un informe

ocasiones porque eso es lo que se ha hecho no nos olvidemos eso es lo que ha hecho el gobierno vasco lo que ha hecho el gobierno vasco y traer a esta cámara un informe que arroja una enorme sospecha sobre la acción

un informe que deja en entredicho la profesionalidad y la honorabilidad de sus agentes y de sus responsables un informe donde queda por los suelos el compromiso y la dedicación

autónoma con la defensa de las libertades y los derechos de los ciudadanos toda esa trayectoria se la carga la pisotea el informe que este

cómo es posible que el gobierno del que depende nuestra policía nos traiga a este parlamento un informe en el que se afirma que esa misma policía está

y malos tratos que además asegura que esas prácticas no quedan aisladas en qué respuesta tendría que darle

no tendríamos que empezar a buscar responsabilidades se va a pedir una comisión de investigación sobre estos sucesos

no se va a pedir responsabilidades a los consejeros anteriores no están aquí pero le iba a preguntar al señor lehendakari y al señor

eran los máximos responsables bajo su dirección supuestamente ocurrieron estos hechos qué pasa

van al margen van en paralelo señorías nuestro grupo considera que el compromiso de la ertzantza con las libertades y los derechos democráticos de todas las personas está fuera

su trayectoria de lucha contra el terrorismo en momentos muy duros y complicados la hemos conocido todos porque la hemos vivido y la hemos sentido en primera persona es una trayectoria

que es quien torturó extorsionó y quien mató en esta tierra no intenten manchar esa trayectoria en aras a una estrategia política irresponsable no busquen repartir responsabilidades sobre la página

querer contentar a quienes siempre estuvieron de parte del crimen y el asesinato a quienes no dejaron ni han dejado todavía de bendecir a eta en ningún momento como les decía al principio ustedes remiten a este parlamento un informe que está inmerso en el juego de la equidistancias

en tratar de tergiversar la auténtica verdad de lo que hemos vivido en este país eta era una organización terrorista que mataba que secuestraba que extorsionaba sean capaces de defender esa realidad

equiparaciones u otros culpables el informe trata de poner en un mismo plano las denuncias de torturas con los asesinatos el acoso sistemático a los policías autonómicos

eta este gobierno no entendemos cómo puede avalar un informe que señala a la ertzaintza

porque con ello este gobierno está dudando de su trayectoria de la trayectoria de las propias instituciones democráticas de la trayectoria de una institución propia como es la ertzaintza de verdad creen ustedes que la ertzantza torturaba de verdad

pueden sostener desde estos escaños del gobierno

su responsabilidad sobre todo la de la consejería de seguridad debería de llevarles a denunciar a rechazar el informe

su honor y su profesionalidad a poner en valor que fueron capaces de dar durante años muy complicados

para defender los valores democráticos de este país incluso algunos su propia vida es importante que lo hagan es importante que lo hagamos porque con ello

que hoy tienen los que ocupan estos bancos eso es lo que pedimos en esta iniciativa

en defensa de los derechos y libertades de todos los vascos que por parte del gobierno vasco y especialmente por parte del departamento de seguridad se defienda el honor de la ertzaintza frente a ataques contra su dignidad

atacados y desamparados porque en ese afán de justificar la teoría del conflicto

a día de hoy todavía siguen justificando y amparando el terrorismo ponen en duda la profesionalidad

manchan su trabajo y su trayectoria y los ertzainas que durante tantos años se jugaron el tipo por defender la libertad y la democracia de los vascos no se lo merecen muchas gracias

el grupo socialista quiere mostrar hoy de nuevo su reconocimiento a la labor desempeñada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y específicamente

para contribuir de forma decisiva a acabar con el terrorismo y defender las libertades democráticas y vamos a reclamar también

realizadas en el informe sobre torturas se incorpore como un informe más de la ponencia y se tramiten en su caso por los mecanismos que este mismo parlamento tiene habilitados para el reconocimiento y reparación de los casos que así de determinaran

porque es de justicia para las víctimas pero es de justicia también para la gran mayoría de funcionarios que respetaron el estado de derecho

por eso pensamos que es un error la forma en la que el partido popular nos trae esta propuesta porque seguro que con la intención contraria en realidad propone el todo con nada

a lo innecesario de reparar a quienes hayan visto vulnerados sus derechos por el uso ilícito de la violencia por parte de algunos agentes y hoy reiteramos nuestro compromiso inequívoco en el reconocimiento y reparación

que hayan sido víctimas de vulneración de sus derechos sea por terrorismo o sea por abusos policiales de cualquier tipo un compromiso que materializamos desde un gobierno socialista

y que ha servido ya para reconocer y reparar a ciento ochenta y siete personas que sufrieron diferentes formas de abusos o excesos policiales incluidas las torturas

desde la oposición para que pudiera salir adelante la ley que ahora está parcialmente suspendida y que se refiere al periodo democrático en ese decreto y en esa ley está el cauce para determinar quiénes pueden acogerse a ese derecho al reconocimiento y la reparación por cualquier forma de vulneración de derechos

incluso por falta de amparo institucional y en el informe recopilatorio al que se refiere la iniciativa

ya reparados por los tribunales otros que podrían ser reclamados todavía hoy por vía judicial puesto que no han prescrito y otros que tienen un cauce para su análisis

ese pensamos que es el camino lo que bajo ningún concepto puede ocurrir es que ese trabajo documental que recoge las denuncias

como una especie de verdad revelada que se dé por acreditado que cada una de las denuncias se corresponde con un abuso y que se asiente la idea de que la tortura ha sido generalizada y sistemática y que sus víctimas son incluso más

los socialistas admitimos que ha habido torturas es verdad y malos tratos y abusos policiales

pero no admitimos que esas normas quieran convertirse en supletorias del poder judicial son medidas de reconocimiento y reparación por procedimientos tasados y contrastados que se fijan en las víctimas no en los victimarios sin ninguna interpretación posible es a ellas a quien hay que dirigirse a quienes sufrieron injustamente por abusos de poder excesos policiales o por indefensión ante sus denuncias a quienes padecieron la actuación de servidores públicos que incumplieron sus obligaciones y les despojaron de dignidad

pero tampoco admitimos que se haga un uso parcial y torticero de esta cuestión los funcionarios que cometieron esas vulneraciones fueron afortunadamente una minoría

que en democracia han sido respetuosos con el estado de derecho porque la labor de esa gran mayoría de servidores públicos fue imprescindible para acabar con medio siglo de vulneración de derechos humanos a cargo de eta también con las bandas que utilizaron a eta como excusa para sus crímenes

demócratas y cumplidores esperan de nosotros que no se les estigmatice por la actuación de otros

con este informe como la hay en otras fuerzas y cuerpos de seguridad

más de trescientos correspondientes a la policía vasca como casos irrefutables sin que haya sentencia efectivamente no hay

ni tampoco en la gran mayoría de los casos que aluden a otros cuerpos y efectivamente la ausencia de sentencia no significa ni muchos menos que no haya habido torturas ni malos tratos

por eso tanto en el decreto que ya ha reconocido a ciento ochenta y siete víctimas y en la ley

se establece un procedimiento preciso y tasado que sin sustituir a la justicia y es preciso reseñarlo

la concreción de la vulneración que se denuncia desde luego lo que no podemos admitir

y está sí que está tasada y acreditada para que entre otras cosas ni les maten ni nos maten y esto es algo por lo que además de remitirse al a comisión de valoración el informe debe incorporarse a los trabajos de la ponencia de memoria y convivencia para que se sumen a las reflexiones abiertas

o las vulneraciones perpetradas con la excusa de eta para que se sumen a las referidas a los trescientos asesinatos sin esclarecer a la reparación de miles de víctimas de persecución al daño todavía sin medir de los niños que sufrieron aquella amenaza a la búsqueda de asesinados cuyos restos no acaban de decir dónde están los autores de los crímenes

cuando cumplan sus condenas reconozcan el daño causado porque en eso estamos por eso reiteramos al pp nuevamente nuestra invitación a que se incorpore a esa ponencia porque buscamos una deslegitimación plena y total del terrorismo y el fortalecimiento del estado de derecho y por eso también vamos a pedir a los proponentes votar por separado los puntos que establecen en su iniciativa quiero recordar

cuando ramón rubial explicaba sus veinte años de cárcel decía todo eso que he visto y he padecido

nunca nunca no quiero que nadie sufra semejantes torturas ni siquiera los torturadores ellos tampoco nadie si esto sirve de ejemplo que vaya por delante el partido socialista ha estado en todo lo que ha permitido avanzar en ese anhelo en cada paso dado en el que empieza a ofrecer respuestas a las víctimas olvidadas

y por eso vemos una oportunidad de seguir diciendo que el estado de derecho ese por el que tanto hemos dado en el pasado que a algunos nos quisieron arrebatar ese que ha ido ganando espacio

legebiltzarkideok egun on guztioi hoy una vez más siento decirlo tenemos un debate inadecuado

y convivencia ez da egokia

gia honi buruz eztabaidatzeko sé que parecemos pesadas pero les hemos dicho

en público y en privado vengan a la ponencia de memoria y convivencia pero no vienen y desde elkarrekin podemos

el lugar y el momento para debatir todo esto es otro participen en la ponencia participen porque su voz es necesaria es necesaria para construir un relato compartido con toda la sociedad vasca

que por compartido de ningún modo renuncia a ser veraz y esto se lo décimos una y mil veces a pesar de que estamos lejos

de esa forma y de esas intenciones cuando traen estos temas al pleno esango dizut

aurrera joan ahal izateko inadecuado también por lo que denota una visión a nuestro juicio

de los derechos humanos cuando ustedes dicen en su proposición que esto es una afrenta

que este informe daña a los cuerpos de seguridad lo que en el fondo están diciendo es que hablar de derechos humanos es inadecuado

pero hablar de derechos humanos siempre es molesto porque no nos hemos puesto nunca de acuerdo en esta cámara pero inadecuado nunca inoportuno jamás

hay que recordar que este informe parte de abundante información

realizados con carácter oficial en los últimos años

documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el país vasco desde el dos mil al dos mil ocho abordaje científico abordaje rigor información archivos informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco mil novecientos sesenta dos mil trece

ramón múgica por cierto exconcejal del partido popular

otro informe de la comisión de valoración sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política

todo informe todos los que he mencionado es siempre mejorable

quienes lo han firmado pero lo que es injusto es que alguien

un simple argumento científico podían haber explicado qué es lo que no les gusta del informe lo han estudiado le puedo dejar

con toda la información a ver dónde encuentra grietas para no poner en valor este informe pero no han sugerido ni qué cambiar ni qué incluir ni qué recomendaciones añadir

a sus afirmaciones es que toda la argumentación que usted aquí ha desglosado parte es cierta pero otra gran parte no se sostiene no se sostiene porque saben que realizar investigaciones científicas para redactar informes oficiales desmontan todos sus argumentos

que es similar como decía elizabeth lira investigadora de la comisión valech de chile es similar al incesto

según el informe de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco de mil novecientos sesenta dos mil trece

ellos referían que hay cinco mil quinientos casos

y le voy a enseñar el documento cuadro resumen de conculcaciones de derechos humanos

de torturas denuncias públicas en el caso del informe vasco

nos hablan de cuatro mil ciento treinta de las cuales doscientos dos

no vemos que en este informe se comparen torturas y asesinatos de eta y si en algún lugar pone

el señor etxeberria fue muy claro a este respecto en la comparecencia y dijo que no es positivo hacer comparaciones con otras vulneraciones de derechos humanos

no hay una neutralidad ética porque ante una vulneración de derechos humanos uno

y aquí sugeriría a todos los de esta cámara es una pena que haya tantas ausencias que cada uno se mire se explore a ver por qué unas vulneraciones de derechos humanos las considera denunciables condenables y dignas de ser

y otras ni siquiera investigadas creemos que se confunden se confunden cuando creen

debilita a la policía al contrario la fortalece la dignifica aún más y ustedes siguen por desgracia sin querer verlo

ya justificaría que se adopten todas las medidas precisas

pero más aún lo que desde hace tiempo está detrás de cada debate sobre las cuestiones de paz y convivencia

por el relato y creo que es pertinente y necesario y deseable dejar clara dos cosas reconocer

no resta un ápice de gravedad al terrorismo de eta

no compensa ni justifica ni contextualiza la violencia de eta en la euskadi del año dos mil dieciocho todavía hay quien cree que esto de la memoria

de un supuesto lado y del otro para ver si así se equilibran unas atrocidades con otras y nada más lejos de lo que debe ser y está siendo hoy la sociedad vasca ve en un lado los derechos humanos

y no quiere que se equilibren quiere que el valor de los derechos humanos supere el peso de la losa de la violencia porque no hay violencias buenas

ni justas ni aceptables la violencia toda la violencia siempre fue injusta siempre fue cruel y siempre fue injustificable

compartamos debe ser el relato que desde mi humilde opinión el otro día un miembro de su partido iñaki oyarzabal en el senado defendió

defendió el reconocimiento reparación y justicia a las víctimas del terrorismo y de vulneraciones de derechos humanos comprometiéndose a sí mismo con la construcción de una memoria que deslegitime

aval o enaltecimiento de toda repito toda forma de terrorismo de toda violencia o de toda vulneración de los derechos humanos ese es el partido popular del país vasco que me gustaría ver

de algo positivo mientras tanto yo insistiré y le volveré a decir a usted y a todos los miembros de su partido

vengan a la ponencia les necesitamos y como dice

prestigioso experto en resolución de conflictos al que hemos invitado a la ponencia de memoria y convivencia hay que acercarse

no solo a las amistades porque acercándonos

podemos llegar a intentar escuchar aquello que no gusta oír y eso que usted nos ha dicho deja claramente en evidencia por qué

pero es que a veces desgraciadamente las verdades duelen eskerrik asko zabala

eguerdion denoi negacionismo fenómeno que se produce cuando un segmento de la sociedad a menudo luchando con el trauma del cambio

en favor de una mentira que le es más confortable

otra conclusión que podríamos extraer es que este trabajo no ha culminado no está cerrado es necesario continuar con este trabajo de recabar testimonios

al cierre del informe paco etxeberria nos confesaba que quedaban cuatrocientos cincuenta y cuatro expedientes pendientes de análisis nos decía

en la comisión de derechos humanos habría más gente que se animaría a denunciar añado que gracias tal vez a la iniciativa del partido popular mañana serán más las personas que se animen que tengan la voluntad que tengan la necesidad de denunciar lo que sufrieron

el impacto que han tenido declaraciones

en la imposición de castigos en la audiencia nacional porque este informe responde a una pregunta qué fue

pero creo que es necesario responder a otra pregunta que es para qué fue la tortura para qué se practicó la tortura

de por dónde responder al marcar tres objetivos que tendría el tormento

primer objetivo castigar a la persona segundo objetivo

tercer objetivo obtener de ella o de un tercero información o una confesión y creo que precisamente aquí está la cuestión y a esto nos apunta precisamente este informe información o confesión

o falsa sobre la que se han sustentado acusaciones operativos policiales

condenas sin ninguna base de veracidad es decir arbitrarias el famoso árbol del fruto envenenado

conlleva una sentencia igualmente irregular arbitraria o ilegítima la verdad judicial la oficial la de la audiencia nacional está contaminada por la práctica

en la extensión en la profundidad que este informe presentado por paco etxeberria y su equipo

sobre cómo ejercer la reparación a estas víctimas cierto que hay decretos hay leyes hoy en día bajo recurso hoy en día inutilizadas por parte del propio gobierno español pero este informe nos llama a encontrar un marco legal adecuado que acoja los derechos de reparación de reconocimiento

de las personas torturadas a las que ahora se les abre un resquicio a la esperanza víctimas que han tenido que

a luchar para ser reconocidas y que hoy encuentran amparo en este informe que como digo todavía merece un desarrollo

los resultados de este informe algunos datos

eminente porque afecta tal vez a algunas policías pero algunos otros datos son dudosos

carecen de autoridad porque tal vez afectan a otras policías que supuestamente no se pueden poner en cuestión no se pueden poner en duda no tiene sentido asumir algunos de los casos que acoge este informe y negar otros cuando el método empleado es idénticamente el mismo cuando sea utilizado el mismo rigor científico

por medio de la prueba documental la prueba testifical la prueba

no vale decir que el mecanismo de verificación empleado el conocido como

para detectar la credibilidad en los casos practicados por la guardia civil y la policía nacional pero no vale para la ertzaintza es eficaz para detectar la veracidad de

a las fuerzas de seguridad bajo mandato español

y como no que señalan a sus responsables políticos o se acoge todo o cae todo por la pendiente resbaladiza

los mecanismos de prevención más aún si se pone en contexto que la ertzaintza actuó durante menos tiempo

practicó menos detenciones bajo incomunicación y la gran mayoría de estas estuvieron vinculadas además al fenómeno de la kale borroka el propio ararteko criticó en diferentes informes el último de ellos del dos mil trece

no cumplía las condiciones que tienen que poseer estos mecanismos de prevención para ser eficaz son palabras del ararteko esto nos insta a reconocer que no funcionaron y nos insta también a mejorar

a establecer medidas eficaces para que ya lo que no se puede restablecer en el futuro al menos se pueda garantizar que no vuelva a suceder

más que devolver este informe al gobierno lo que nosotros instamos es a ponerlo en valor y sobre todo a adoptar estas recomendaciones para desarrollarlo

erakundeek lean el informe señora llanos léanselo el tribunal europeo de derechos humanos de estrasburgo ha condenado en nueve ocasiones al estado español por no investigar denuncias de tortura en ningún caso

y qué han hecho ustedes ante eso qué ha hecho el gobierno español ante eso qué ha hecho el partido popular ante eso sus condenas genéricas de hoy a la tortura en abstracto

vacías señora llanos lean el informe naciones unidas consejo de europa

expreso y reiterado al gobierno español que preside y dirige su partido en ningún caso al gobierno vasco ni a la ertzaintza lean el informe señora llanos

ha condenado a españa por malos tratos ante una doble denuncia de tortura

y cuál es su reacción ante esa condena por todos estos motivos reiteradas condenas incluidas el plan de paz y convivencia planteó la necesidad de una investigación sobre la tortura en dos mil catorce el gobierno vasco encargó este estudio al instituto vasco de criminología de la upv

que nadie hasta el momento ha puesto en duda el gobierno vasco ha hecho exactamente

pero permítame reiterarle que no es el gobierno vasco quien desde hace años está siendo interpelado por las instituciones de derechos humanos permítame reiterarle la desazón sino la vergüenza que produce que el gobierno español que sí ha sido interpelado y condenado no atienda estas recomendaciones internacionales y no solo eso además se permita

se agotan en la vía judicial y en los casos resueltos la del impuesto

o van más allá de las evidencias judiciales qué cree usted señora llanos

para decir una cosa y su contraria primero implican falsamente a la ertzaintza y luego se escandalizan por ello primero tratan de ensuciar su prestigio y luego dicen que hay que limpiarlo

ustedes sin importarles nada de lo que se llevan por delante y no pretendan contar con nuestro voto para ese juego señora llanos

y cuatro razones sustentan al respaldo mayoritario de la ciudadanía vasca primera

decisivo en la lucha contra el terrorismo y seguirá jugándolo en defensa de la convivencia y de la democracia segundo

un alto precio por su compromiso en esta lucha por la defensa de la paz y la convivencia y lea sino el informe sobre la injusticia padecida por el colectivo de ertzainas y sus familias

encargado también por la secretaría de

del gobierno vasco tercera razón la ertzaintza ha demostrado su disposición a la transparencia la auditoria y también la autocritica y esta actitud señor llanos no solo no debilita a la institución de la ertzaintza sino que la honra y la engrandece

y esa es precisamente la diferencia entre ustedes y nosotros entre su gobierno y el nuestro y cuarta razón

que en materia de derechos humanos está a la cabeza en europa y en el mundo una prueba objetiva son precisamente los mecanismos y protocolos preventivos para evitar espacios opacos en el trato con personas detenidas insisto

no hagan demagogia no tergiversen y no manipulen

garantizar a sus víctimas los derechos a la verdad la justicia y la reparación no suponen una afrenta democrática de ningún modo es una obligación y es un compromiso con la democracia y la convivencia lo contrario no investigar

no garantizar los derechos de las víctimas eso es lo que repugna a las sociedades decentes y avanzadas dónde hay señora llanos en este informe una sola equiparación

y el terrorismo de eta le emplazo a que señale un solo punto en el informe

lea los informes y las recomendaciones internacionales de derechos humanos la investigación de la tortura y su denuncia es un ejercicio de compromiso democrático

y fortaleza también el terrorismo de eta y termino haciendo mía la reflexión de la portavoz del grupo popular en la comisión de derechos humanos

y decía así tenemos un deber moral de no olvidar entonces la pregunta es qué hacemos con este informe del que nadie duda de su veracidad

de su excelencia esa es la pregunta que como políticos tenemos que contestar

responda usted a esas preguntas qué hacemos no ya con este informe sino con la oscura y dura realidad que ha puesta en evidencia qué décimos señora llanos

señora llanos convendrá conmigo en que tenemos el deber moral de no olvidar y de contestar

admitir la evidencia responder a las víctimas que han sufrido y asumir el compromiso de que esta oscura y dura realidad no se produzca nunca más en euskadi por eso no podemos votar

gracias de nuevo señora presidenta un par de precisiones al señor iturrate

en primer lugar que dice que el gobierno de españa no ha hecho nada ante las

contra la tortura de la onu manifestó claramente que no existe en españa un problema sistemático de tratos inhumanos o tortura y en su informe el comité europeo para la prevención de la tortura señaló que la cooperación recibida por parte de la administración española fue excelente teniendo la delegación un acceso rápido a los lugares de detención pudiendo reunirse sin testigos con todas esas personas que quisieron hacerlo y se facilitó toda la información solicitada y con relación a si nos hemos leído o no leído el informe

que el comité contra la tortura de las naciones unidas realizó tres dictámenes condenatorios por no investigar y no castigar uno de ellos

le digo pero bien yo no

niego señora zabala que haya habido torturas y nuestra condena a la tortura

que determinadas afirmaciones que hacen algunos grupos políticos están cargadas de pesos y las que hacemos otros

condenado la tortura de manera contundente y clara siempre siempre

están todavía tienen abierto la vía judicial y evidentemente si esos casos se prueba judicialmente

absolutamente esas actuaciones y no tenemos yo no tengo ninguna patología

no lo hemos negado en ningún momento ni tenemos ningún temor y mucho menos a la verdad los que parecen tener temor a la verdad son otros son otros los que durante mucho tiempo y todavía a día de hoy siguen sin condenar

evidentemente no hemos oído ninguna condena ni los que estaban mirando para otro lado

algún miedo a la verdad este grupo ninguno ningún miedo a la verdad

para que es necesaria la retirada de este informe que deja claro que el gobierno vasco no puede avalar un informe como este le ha dado el representante el señor arzuaga el representante de bildu

es el mejor argumentario de por qué este informe es absolutamente rechazable de por qué el gobierno vasco no se puede quedar con los brazos cruzados ante un informe como este

y usted bueno por las palabras que ha dicho señor iturrate también usted avala que esos trescientos treinta y seis casos que aparecen

porque usted ha avalado el informe total y absolutamente el contenido de ese informe luego si avala el contenido

los testimonios que aparecen reflejados en ese informe usted está avalando como grupo que apoya al gobierno está avalando

en trescientos treinta y seis ocasiones infringió malos tratos

avalando su gobierno y nosotros

claramente porque sí pone en cuestión la trayectoria

porque detrás de este informe existe un interés político claro

que domina el ambiente de la ponencia de paz y convivencia y que por eso el partido popular no va a la misma no asiste a la misma

a un grupo político que a día de hoy como digo siguen sin condenar el terrorismo porque estas actuaciones irresponsables lo hacen para contestar a quienes

a quienes justificaban que se les quemasen dentro de una furgoneta o que se les diese una paliza porque la ponencia de paz y convivencia es a una construcción del relato a eso es a lo que está a una construcción del relato y no al que debiera de ser su objetivo que es la deslegitimación del terrorismo en este informe contienen acusaciones muy graves no solamente para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado señor iturrate

también esa teoría del ventilador esa maniobra del ventilador que gusta tanto en la ponencia de paz y convivencia

la que se traslada aquí a todo el parlamento con la presentación y la emisión del informe

a debatir es de verdad el gobierno vasco se va a quedar de brazos cruzados cuando se está acusando

en trescientos treinta y seis ocasiones de torturas y malos tratos de verdad no va a hacer nada de verdad

a un espectro político que todavía a día de hoy no ha condenado la vulneración de derechos humanos más graves sucedida en este país que fue el terrorismo de eta para contentar a esos no le importa llevarse por delante ni el prestigio ni la trayectoria ni el trabajo de la ertzaintza durante mucho tiempo y del resto de fuerzas y cuerpo de seguridad del estado eso es lo que se hace

es la que no le importa hacer con tal de contentar a algunos pues yo

sino que vuelvo a pedir reiteradamente que este informe sea retirado porque pone en cuestión el estado de derecho porque ponen en cuestión las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y porque pone en cuestión

el gobierno vasco no debiera de permitir eso eskerrik asko llanos anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da

de lo que se ha querido evitar en la ponencia de memoria tratar de conseguir consensos a la hora de fraguar una memoria compartida lo más posible y no convertir esto es una especie de rifirrafe

a cualquier vulneración de derechos humanos y el apoyo a las medidas de reparación

afectada por esta situación y no nos dejamos arrastrar por el pp

pero nos parece injusto que se pretenda dar una imagen

generando la sensación de que todos son una especie de cabestros que han hecho de su capa un sayo

es verdad porque como decía antes ni es cierto que todos han sido torturadores ni es cierto que por otro lado no haya habido torturas en cualquier caso

y un espacio de sentido común en el que todos tendríamos que trabajar porque

del informe lo que hay que reconocer es que lo que hace

testimonios y casos concretos no son sentencias judiciales en ningún caso pueden serlo por eso nosotros décimos que ese informe vaya

allí se analice se ponga en marcha a través de la comisión de valoración un estudio sistemático de cada uno de ellos y en muchos de ellos que tienen abierta la vía judicial que se recurra por supuesto a la vía de reclamación judicial que la tienen abierta

y rechazar también generalizaciones injustas porque nosotros sí seguimos apostando por la ponencia de memoria solo una precisión señora llanos el asunto central de la ponencia de memoria no es ese que dice usted el relato es la memoria

de la ponencia ha estado dedicada a escuchar a las víctimas a escuchar su testimonio sus vivencias su dolor su problemática y eso

el suyo y será individual e intransferible pero sí a rescatar la memoria de todo lo que ha ocurrido en este país esa y no otra desde luego es la intención del grupo socialista

eskerrik asko presidente andrea oso zuhurra izango naiz voy a ser muy prudente no sé si con este informe y con otros muchos informes

no me atrevo a decir si la tortura ha sido sistemática esporádica

rechazada ensalzada lo que sí digo con contundencia y con firmeza es que la obstrucción en el esclarecimiento e investigación

afectan a la prevención de la misma y a la reparación

y sí quisiera poner en evidencia y recordar que los dos gobiernos del partido socialista y dos gobiernos del partido popular fueron los que indultaron a toda esta serie de personas

en el informe en la página trescientos veintisiete para recordar zer egiten da zer lortzen da

y eso se lo digo con experiencia y con todo el cariño del mundo pero

hay diferentes memorias aquí hay diferentes experiencias y diferentes vivencias y también me gustaría resaltar la labor que tiene y la responsabilidad que tiene el partido popular en este sentido

evaluó al estado español el diálogo y las conclusiones hacían referencia a todas esas

pues sabe que ningún medio de comunicación lo publicó esto mismo lo dijo

de junio de dos mil dieciséis quiero poner en valor que en este curso

habló desde el departamento de seguridad del gobierno vasco de los mecanismos de prevención de la tortura

aldecoa jefe de la ertzaintza sabe que ha habido casos de tortura

y es digno de poner en valor que la ertzaintza haga

me gustaría ver y observar que las fuerzas de seguridad del estado

como la policía nacional aprenden de unos comportamientos y de unas buenas prácticas

qué consecuencias deben de tener esos responsables políticos de aquella época

un pequeño homenaje a todas esas personas porque este informe que yo les he enseñado

de personas que han sufrido mucho como otras muchas en este país que se ven reflejados otros sufrimientos en otros informes que nadie pone en evidencia porque son realidades que han existido y eso es lo que

todas esas realidades que es necesario reconocer para poder construir

una euskal herria en la que todos nos sintamos satisfechos y sepamos que se garantizan el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas hoy por hoy pongo en duda al igual que he dicho que no me atrevo a decir si la tortura es sistemática esporádica deliberada rechazada o ensalzada hoy por hoy

y respetan y garantizan los derechos humanos de todas las personas vascas eskerrik asko

la famosa lucha por el relato que a algunos preocupa hasta a la obsesión

porque según la teoría de la señora llanos estaríamos seguramente ante la mentira colectiva la mentira

seguramente la mentira más grande que se ha construido en la historia mejor aún se rechaza la realidad de la tortura porque presuntamente favorece al relato o al discurso de la izquierda abertzale es decir

eminente la verdad que traslada refuerza nuestro discurso bueno estamos de enhorabuena nos congratulamos

es veraz y retrata la verdad en tres facetas la verdad innegable de las personas que murieron

justicia poca verdad imagino que serán los veinte casos que condena el pp

a sus perpetradores guardias civiles policías nacionales pero también la verdad que nos transmiten esos

se investigaron algo que es coherente además como se ha denunciado

nueve ocasiones en las que el tribunal europeo de derechos ha condenado al reino de españa y también contra la tortura de naciones unidas en otras cuatro uno de estos caso precisamente relativo al caso arkaitz gallastegui de responsabilidad de la

lo ha mencionado y lo ha puesto en valor la señora llanos lo conozco bien señora llanos porque yo mismo fui el que interpuso aquella denuncia ante el comité de tortura de las naciones unidas el señor iturrate nos decía que claro en comparación fueron mejores los sistemas de prevención puestos por la ertzaintza que aquellos puestos por la guardia civil o la policía nacional es decir fueron mejor que nada porque la guardia civil o la policía nacional

y es cierto y le reconozco que algo se intentó hacer algo cosmético

como el propio ararteko lo puso en cuestión y me pregunto si es realmente a eso a lo que optamos es decir a ser algo mejor que la guardia civil y la policía nacional porque yo tengo más expectativas

yo tengo más expectativas yo tengo más aspiraciones y porque no queremos

imponga un modelo diametralmente opuesto

traslade el debate de la negación y me pregunto lo que les parecería si nosotros negaríamos los hechos que habitualmente se nos imputan

su autoría negar su responsabilidad negar su gravedad sino negar

existencia sería un escándalo y yo creo que hoy estamos ante un escándalo ante la intención de negar

y yo lo entiendo porque lo hacen los nazis negando el holocausto

lo hacen los supremacistas blancos americanos negando el genocidio

y alguien ha pensado por qué no teniendo además cierta afinidad

no será negando la verdad ocultando los hechos que además interpelan a nuestra responsabilidad como construiremos una memoria inclusiva

sigue apostando por la ponencia pero creo que

y no es la mejor manera de dar lecciones en el reconocimiento del daño injusto

tomo nota y aprendo rápido y decía que sí que

es contagioso el negacionismo del pp y no sé cómo nos vamos a fiar señor pastor en la ponencia cuando

del partido popular algo que estaba contrastado y que estaba comentado entre nosotros para no dar más pábulo para no darle más aire para que no siga trayendo este tipo de iniciativas y ustedes rompen

si echan continuos capotes al pp para que no se queden solos no sé cuál va a ser la gestión que vamos a poder hacer de la ponencia amaitzen dut

decía que dice el señor iturrate que la ertzaintza impulsó y estableció mecanismos de prevención

lo dice el informe y lo dice el informe además recogiendo

y la ertzaintza y el gobierno vasco están comprometidos con la mejora

de todos los derechos incluidos los derechos de los detenidos y el encargo mismo del informe por parte del gobierno vasco y el sometimiento a esta deformación a la que nos ha traído el partido popular es la mejor prueba de ese compromiso y de esa

un informe por cierto señora llanos reitero que en ninguna de sus más de quinientos páginas hay

no tienen ningún rubor en seguir manteniendo esa tesis vergonzosa

es que no hay ni una sola mención a ello ni una sola ni implícita ni explicita pero les viene bien les viene bien para enfangar les viene bien para mantener esa tensión en la que ustedes se manejan de maravilla porque usted no pretende

lo que pretende es enfangar el terreno para ocultar su falta de compromiso la falta de compromiso del partido popular la falta de valentía del partido popular la falta de compromiso con el respeto a los derechos humanos del partido popular

que les lleva incluso a que hoy la señora bengoechea no esté presente

salón de plenos mesedez isiltasuna zuen eduki duzue zuen momentua mesedez isiltasuna ese es precisamente este es precisamente el ejemplo

usted decía señora llanos que domina el informe la acusación y la equiparación mire yo le digo que no es de recibo lo que está haciendo usted y lo que está haciendo el partido popular que no es de recibo decir que

es hacer el juego a eta porque decir eso es estar manteniendo que es mejor ocultar la realidad

que es mejor revictimizar a las víctimas y no importa que luego tengan que desautorizar a su portavoz o que el presidente de su partido en un debate electoral se tenga que callar

de otra candidata pregunta usted si de verdad el gobierno vasco se va a quedar con los brazos cruzados ante la

implementando políticas de prevención va a seguir mejorando los métodos de la ertzaintza

con los derechos humanos la pregunta es qué van a hacer ustedes qué está haciendo cuál es la respuesta del señor catalá del señor rajoy

salvo la señora bengoechea qué es lo que van a decir ustedes ante

los más de tres mil casos que denuncia isiltasuna cuál es la postura

del señor catalá y del gobierno popular cuando hay una denuncia la última denuncia del tribunal de derechos humanos de estrasburgo van a seguir ustedes metiendo la cabeza debajo del ala

la realidad humillando y revictimizando a las víctimas esa es la respuesta que tienen que dar ustedes desde luego

usted pretende enfangar el terreno enfangar el terreno para ocultar su falta de compromiso y la falta de compromiso de su gobierno

y su desidia con el fenómeno de la tortura y además lo hacen ustedes con una falta de coraje

pasmosa porque no fueron capaces ninguno de los que están aquí ninguno de los portavoces habituales del partido popular

y decirle lo que usted ha dicho aquí y mandaron a la señora bengoechea para desautorizarla al día siguiente

cuando llanos andrea isiltasuna y mandaron a la señora bengoechea

o sea no solamente ustedes pretenden enfangar el nombre de la ertzaintza

y en eso no van a contar con nosotros nada más eskerrik asko iturrate jauna zurea da hitza bai sémper jauna

dirigido quiero solicitarle formalmente que retire esa expresión de la falta de compromiso del partido popular con los derechos humanos por ser profundamente injusta además de una rotunda mentira

vemos una progresiva incorporación de las mujeres en el trabajo asalariado pero aparejado a una discriminación salarial

por sexos es de uno coma cinco a dos pesetas de diferencia

que para tener en cuenta la cuantía sería comparar que en aquellos momentos

en la década siguiente el jornal medio femenino viene a representar también la mitad y aún menos que el salario masculino

pero por otro también para impedir que las obreras se puedan convertir en trabajadoras con las mismas características que las de los varones es una decisión consciente

el salario de una obrera metalúrgica era un cuarenta y uno coma tres por ciento menos que de un obrero metalúrgico y en el sector textil la diferencia era de un cuarenta y siete coma seis

el salario máximo que podía cobrar una mujer nunca llegaba al mínimo que iba a cobrar un hombre por ese mismo trabajo y si bien la república supone una efímera mejora de los derechos

que básicamente supone una renuncia del trabajo para la mujer del trabajo asalariado eta erregimen horretan frankismoan errepresio bortitza erabili izan zen

pizgarriekin batera las limitaciones de las mujeres exclusivamente dedicadas a las tareas reproductivas

que señalaba como una conquista para el nuevo régimen el del franquismo que el estado prohibía el trabajo nocturno de las mujeres y niños esta prohibición del trabajo nocturno se extendió a lo largo de muchas décadas y ha sido otro de los obstáculos objetivos para que la mujer pudiese trabajar en igualdad en la industria de la misma manera

libera cierro comillas a la mujer casada del taller y de la fábrica mila bederatziehun eta berrogeitik aurrera lanaren inguruko araudiak reglamentaciones del trabajo

es cierto que se produce un cambio a principios de los sesenta la ley cincuenta y seis

a partir de una proposición elaborada por la sección femenina en ella se aplica la igualdad de salarios hizo desaparecer la excedencia forzosa en el trabajo por razón de matrimonio y aunque mantenía la autorización previa del marido se consideraba que el permiso estaba concedido de hecho cuando la mujer trabajaba previamente al matrimonio

la mano de obra femenina se caracteriza también durante años por su bajo nivel de capacitación profesional

en mil novecientos setenta las mujeres asalariadas alcanzaban el cuarenta y seis coma tres por ciento llegando al sesenta coma siete por ciento en mila bederatziehun eta laurogeita hamar pero el aumento del número de trabajadoras

que su presencia se produzca de la misma manera en todos los sectores en las actividades industriales

estaban una cuarta parte de las trabajadoras en mil novecientos noventa se había disminuido al dieciséis coma cuatro por ciento emakumeen egoera lan merkatuan

en dos mil trece también se revisaron todos los libros de texto de los grados de primero a octavo para eliminar los estereotipos y para desarrollar la conciencia de igualdad de género

y en los libros de historia también se discute la igualdad de género

otros países han tomado otro tipo de medidas que tienen que ver también con formar al profesorado para reconocer y afrontar sesgos o prejuicios otros también educan a los equipos de orientación y en todos los casos lo que sí está claro de las decisiones que han tomado los sistemas educativos es que no recuden su actuación a apoyar

sino que plantean además una revisión crítica de la cultura y normas masculinas entre niños jóvenes y adultos hombres en un campo

masculino como causa de la discriminación a mujeres y niñas además hablar

y nada se podrá dar y desde luego no somos irruptivos e innovadores introduciendo a las mujeres estamos muy lejos de la igualdad

se decía que la paridad se alcanzaría en ochenta y uno años en el dos mil noventa y cinco pero con datos actualizados al año siguiente de dos mil quince se retrasaba a ciento diecisiete años los necesarios para alcanzar la paridad en qué se basaban aquellos estudios pues en diferentes

que nos cuesta a las mujeres mucho más conseguir una promoción que a los hombres el llamado techo de cristal

que normalmente además las mujeres y en mayor medida que los hombres tenemos que demostrar que somos capaces de hacer nuestro trabajo y no solo al inicio sino a lo largo de toda nuestra carrera profesional

es menos concreto menos accionable y está más enfocado a cuestiones de personalidad no se

por lo que hacemos sino por cómo somos y también un hecho curioso hay sectores como el de las tic

viene disminuyendo de los años noventa hasta ahora y la desconexión

solo se gestiona aquello que se mide y por ejemplo no hay datos de la comunidad autónoma tenemos los datos de europa cuando se realizan estudios qué se mide bueno en un setenta y seis por ciento de los estudios se mide el número de mujeres que están en los equipos de dirección pero sin embargo no se miden cuestiones como el grado de retención de empleados por género solo se mide en un treinta y dos por ciento los estudios la brecha salarial solo en un veinticinco por ciento la proporción de solicitudes de mujeres

y cuál es la repercusión financiera de los equipos de dirección que tienen mujeres

y por cierto dan resultados muy positivos lo que no se mide no existe tampoco hay planes de seguimiento de la carrera profesional

solo un dieciocho dentro de las organizaciones también la percepción y la perspectiva están desconectadas por géneros cuando se pregunta a hombres y a mujeres dentro de la industria cuáles son las razones para no alcanzar los puestos directivos

porque hay escasez de candidatas mujeres opinan un cuarenta y dos por ciento de los hombres pero solo un siete por ciento de las mujeres porque hay conflictos para simultanearlo con la familia

porque hay un sesgo en la propia organización dicen solo un quince por ciento de los hombres y un veintiocho por ciento de las mujeres estamos bastante de acuerdo en que es la cultura de valores que es preponderantemente masculina en un veinticinco por ciento y un veintiocho por ciento de los casos

y lo que se hace los sectores las organizaciones empresariales están de acuerdo en el valor de la diversidad en que hay pocas mujeres pero eso no va acompañado de medidas concretas hemos visto las causas hemos visto la historia hemos visto los reglamentos hemos visto la cultura de empresa

la autoexclusión en el empleo le demostramos que se equivocaba porque no es así

porque no son tendencias son imposiciones culturales sobre las que hay que actuar y las mujeres dónde están se preguntan a veces emakumeak non daude eta hau guztia

gracias señora presidenta efectivamente señora larrion compartimos los argumentos que usted ha dado aquí y yo por dar algún dato más

donde dice que las mujeres vascas se encargan del sesenta y siete por ciento de las ocupaciones peor remuneradas de todo el mercado laboral

auxiliares de enfermería categoría nueve servicio doméstico principalmente los salarios medios que corresponden a estas categorías están a la cola de la escala

un cuarenta y uno por ciento del total de la fuerza laboral femenina

laboral pero por el contrario los hombres son aplastante mayoría en las categorías siete y ocho relacionados con la industria y la construcción donde apenas hay rastro femenino

medios rondan cuotas mucho más altas

está claro es masculina ahí reside una de las claves de la desigualdad salarial de género las mujeres vascas

mientras que predominan en los servicios donde el sueldo medio es un veintiséis por ciento inferior desde el área laboral de confebask virginia múgica decía que llevamos años con campañas para orientar a las mujeres hacia la formación

divulgando entre otras herramientas el estudio de trayectorias de mujeres que han cursado estudios de fp en ramas técnicas pero resulta complicado vencer determinados estereotipos muy enraizados en la sociedad y en el ámbito

esto es muy perjudicial para la competitividad porque el talento no está en el sitio que debería e influye en la elección que las chicas hacen a la hora de formarse

siendo mayoría femenina en las universidades vascas

según lanbide otra categoría laboral con alta población laboral femenina es la categoría dos que corresponde a médicas enfermeras abogadas

están en esta categoría un veintiocho por ciento categoría que en gran medida forma parte del empleo público de euskadi en un sesenta y uno por ciento

pero el sector público no compensa la oferta desigualdad del sector privado y además en el sector público también las mujeres son mayoría en los puestos de salario más bajo menos cualificado como son limpieza

etcétera la conciliación sigue en manos femeninas ellas son las que solicitan

por qué trayectorias de estudiantes mujeres brillantes en secundaria y selectividad luego eligen profesiones

y con peor salida profesional solo un quince por ciento de las en selectividad

y cuáles son los factores hay muchos estudios y yo creo que todos coinciden en que las decisiones que se toman a la edad de comenzar la universidad están basadas en mayor o menor medida con los estereotipos en los que uno quiere proyectarse

qué nos dicen que los informáticos o los ingenieros siempre son hombres desaliñados aislados raros y poco atractivos

aeronáutica un estudio que se hizo en las universidades de

exponía que las niñas a partir de los seis años evitan realizar algunas actividades técnicas con el pretexto de que ellos las hacen mejor porque son más inteligentes las contribuciones de las mujeres que trabajan en estos campos se invisibilizan y

los jóvenes carecen de figuras con las que identificarse pocas veces se expone la contribución de las mujeres científicas en los campos de las ciencias puras y la tecnología solo un ocho por ciento del profesorado de las facultades de ingeniería es femenino según el último informe científicas en cifras

no solo faltan referentes femeninos en el imaginario popular y cultural sino

además persiste cierto sesgo de género que insiste en que las mujeres estamos más dotadas para los trabajos que conllevan los cuidados comunicación

al resto de la sociedad esta opción es tremendamente valiosa pero puede ser

y mujeres si el futuro está en manos de la robótica y de la programación por qué no dejamos que nuestras hijas

sean entre las mejor preparadas o estén lo mejor preparadas posibles la

avisaba a españa de que la proporción de mujeres que eligen carreras relacionadas con las tecnologías de la información y de la comunicación es solo del doce por ciento frente al diecinueve en el conjunto de países

recordaba que los estudios superiores en ciencias tecnologías ingenierías y matemáticas son clave para el crecimiento económico de un país y para su innovación en españa

y arquitectura en los últimos diez años ha bajado un ocho coma tres por ciento para adaptarla a la demanda en las universidades públicas españolas

sin embargo en las universidades privadas es de un cuarenta y tres por ciento de mujeres profesoras hace un mes ha habido un foro

y han puesto el acento en animar a las mujeres a optar por una de ellas en las que solo el veinticinco por ciento de cuatro estudiantes es mujer y en algunas el porcentaje baja al doce por ciento los expertos participantes en este foro

los más demandados por las empresas y que la falta de interés ha disminuido entre los jóvenes europeos esto es una contradicción tremenda

frena a los y las estudiantes a cursar los estudios de profesiones técnicas y científicas y han añadido que en realidad no hay que tener un expediente brillante para estudiar ingeniería física o matemáticas

motivado y querer hacerlo se trata de un ámbito que los estudiantes desconocen y que

en ciencias en tecnología en ingeniería y matemáticas por ejemplo

no hay que tener un expediente brillante estos ejemplos creo que es bueno que se repitan

la educación que solo hay que ser motivado y uno de los aspectos que más frena la apuesta de los jóvenes en estas carreras es como decía antes el miedo al fracaso que en el caso de las mujeres se está acusando la coordinadora del proyecto hypatia y bióloga del área de investigación ha afirmado que las chicas

tan buenas calificaciones como los chicos pero tienen una autocensura mayor y el objetivo es romper estos estereotipos en torno a las carreras por lo que es importante comunicar las ciencias de manera

ha sido la enmienda que nosotros presentamos a la iniciativa que presentaba eh bildu nosotros decíamos como primer punto que el parlamento vasco instara al gobierno vasco a que junto con los agentes implicados en el sector industrial y el área de educación

en los grupos de toma de decisiones o en los grupos de calidad e innovación en órganos de representación en el ámbito empresarial así como

esto nos parece importante hacer un diagnóstico pero que también participe el área educativa porque nos parece que es en el ámbito donde falta trabajar muchísimo

y sobre la base de las conclusiones de ese análisis realizado diseñen un plan estratégico con medidas dirigidas a aumentar la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos

empresarial que se adapten a los nuevos tiempos son antiguos antiguos

como el que decía yo de estudio de trayectorias de mujeres que han cursado estudios de fp en ramas técnicas y que se divulguen en el ámbito educativo

acordado pero bueno yo creo que es una enmienda muy potente que hay un acuerdo importante entre todos los agentes socioeconómicos implicados tanto en el ámbito educativo para

también en esa enmienda de transacción instamos al gobierno vasco a que basándose en el plan de acción realizado diseñe junto con los agentes implicados y apruebe durante

e igualmente a que revise y actualice los estudios manuales realizados con anterioridad con esa misma finalidad también instamos al gobierno vasco a que tanto en el plan de acción o en el plan estratégico

planificación detallada de propuestas de estimulo destinadas a atraer un número mayor de mujeres especialmente jóvenes a estudios inscritos en las ramas

tanto de formación profesional como de ámbito universitario u otros
también instamos al gobierno vasco amaitzen joan ocariz andrea que en el marco de debates del plan de acción y del plan estratégico se evalúe

la viabilidad jurídica y de la conveniencia de establecer cuotas obligatorias de mujeres en los consejos de administración de las empresas

de las empresas garantice que dicha representación sea paritaria instamos en el punto seis

para aumentar y visibilizar la presencia de mujeres en igualdad en todos los seminarios charlas

el parlamento vasco insta también a aumentar la presencia de mujeres en la industria que impulse medidas económicas sociales para avanzar en la igualdad retributiva promover la transparencia salarial de las empresas combatir la discriminación salarial

que promuevan medidas para la conciliación de la vida personal familiar y laboral

desde nuestra coalición desde elkarrekin podemos saludamos la transacción que hemos firmado todos los grupos

de eh bildu porque en primer lugar más allá de que por supuesto perseguimos los mismos objetivos que se plantean en la iniciativa original nos parece que en este caso

por unanimidad implica también una obligación entre comillas extra para el gobierno en el sentido de que tendrá que llevar a la práctica

lo que hoy finalmente hemos acordado a nosotros esto nos parece importante porque creemos que la iniciativa recoge

como potente yo lo comparto aunque luego es verdad que luego a la hora de llevar a la práctica lo que hoy aprobamos también hay diferentes maneras de llevar a la práctica

nos parece que es necesario que haya un plan estratégico que persiga estos objetivos

estamos de acuerdo también con que haya un plan de acción más concreto como recoge

sí que es verdad que nosotros pensamos que la parte más interesante es la de un plan estratégico porque nos parece que esta es una cuestión

y creo que las razones de por qué las han dado también las compañeras que han intervenido

anteriormente a mí esto no se resuelve de una manera rápida desgraciadamente pero es un problema que tenemos

donde el cincuenta y uno por ciento de las personas son mujeres

al veinte por ciento esto no puede ser pero es que además efectivamente hay un problema

en nuestro modelo productivo son aquellos sectores con mejores condiciones de trabajo y son aquellos sectores donde hay salarios más altos por eso no es casual es precisamente en estos sectores donde hay menos presencia

larrion ha hecho una descripción histórica que yo comparto bastante acertada de estas cuestiones y las consecuencias

la famosa brecha salarial de la que tanto hablamos afortunadamente hablamos porque existe y si existe hay que hablar de ello y sobre la que algunos incluso en ocasiones muestran dudas

de la insistencia de esa potente brecha salarial en el caso de euskadi es precisamente esta que en estos sectores donde el salario más alto hay

más del ochenta por ciento son hombres y por el contrario en los sectores

la mayoría de las trabajadoras son mujeres por lo tanto entendemos que es una carrera de fondo y nosotros queríamos poner por intentar no repetir demasiado el foco

que también en las otras enmiendas y en la propuesta original se abordaba esta cuestión la cuestión educativa porque aquí hay un problema previo al de la infrapresencia de mujeres

que es la infrapresencia de mujeres en las ramas educativas que están destinadas precisamente a las salidas laborales

difícilmente vamos a poder conseguir superar ese porcentaje del diecinueve coma veinte por ciento de presencia de mujeres en la industria si tenemos una presencia

de las y los trabajadores de la industria provienen precisamente

una cuestión muy importante pero también es verdad que no es solo en el sistema educativo en estas ramas es en el conjunto del sistema educativo porque efectivamente el problema de raíz son

aún hoy en día mantiene nuestra sociedad y que le relegan a la mujer todavía hoy en día aunque ya no se diga de manera explícita

pero están ahí de forma implícita sigue existiendo y sigue existinedo no solo la discriminación sino

que lleva a la mujer todavía le otorga ese papel reproductivo en nuestra sociedad

nos parece que esto necesita un plan a medio largo plazo nos parece que el plan estratégico es más importante que el plan de acción concreta que nos parece estupendo y que nosotros también

lo vamos a respaldar nos parecía importante también está recogido por supuesto contar con los agentes nosotros siempre décimos esto pero en esta ocasión

que aunque es muy importante contar tanto con la patronal como con los sindicatos

tienen trabajado esta cuestión y también tienen propuestas pero hoy voy a poner otra vez el foco en los profesionales de la educación porque también los profesionales de la educación

en repetidas ocasiones sobre este asunto porque es verdad que esto tampoco es nuevo es verdad que se han hecho cosas en el pasado

y seguramente nos acaba de dar con la clave porque esto necesita abordarse

integral porque es una responsabilidad del conjunto de la sociedad porque seguimos teniendo todavía esa mentalidad machista y patriarcal que nos lleva a que finalmente las mujeres que no tienen que demostrar ya esa preparación porque están demostrando

estos planteamientos pero es verdad que luego a la hora de elegir las ramas de salida los profesionales del sistema educativo se encuentran con que

y esto viene porque seguimos asumiendo que las mujeres tienen que ir a determinados empleos

un tercer punto que finalmente no ha sido recogido porque no se centra tanto en la cuestión

no podemos aceptar que haya sectores menos precarizados y sectores muy precarizados

la relación que existe entre los sectores más precarizados y la feminización que tienen está íntimamente vinculada precisamente a la elección de las mujeres a la hora de no estar yendo a las ramas

que también por supuesto incide que es una alta rotación en los puestos de trabajo una alta temporalidad

y aquí se ha dicho las mujeres cubren suponen el setenta por ciento de los contratos parciales y estos sectores más precarizados

en los que se permite que haya esa alta parcialidad lo que están diciendo es las mujeres tienen que ir a estos sectores porque las mujeres

porque son las que se tienen que dedicar a las tareas reproductivas en un momento determinado de su vida y durante toda su vida

vinculado y pensamos que hay que luchar también contra la precariedad en estos sectores sobre todo en ese sentido de la temporalidad la parcialidad y la alta rotación

en los puestos de trabajo seguramente esto da para otra iniciativa y no desviamos hoy el foco de la necesidad que tiene

nuestro modelo productivo y nuestra sociedad de que haya más presencia de mujeres en el mismo y que esta presencia

como mínimo los niveles de cincuenta cincuenta y uno por ciento porque el cincuenta y uno por ciento de nuestra sociedad son mujeres nosotros por lo tanto estamos de acuerdo con la transacción

a la que se ha llegado y esperamos que el gobierno vasco

con el voto de todas y todos los que estamos aquí la ponga en marcha y que todos los grupos también estemos pendientes de cómo la pone en marcha porque seguramente ahí es donde también encontraremos

el grupo socialistas vascos comparte con la proponente y con el resto de grupos parlamentarios la propuesta digamos de acuerdo que se ha firmado y que se va a presentar hoy aquí y que estamos debatiendo

muchos datos y yo creo que lo importante de la iniciativa es que compartimos un diagnóstico y creo que llegar a acuerdos en lo que es el diagnóstico

el señor hernández yo creo que si hay algo que llama realmente la atención respecto a la presencia de la mujer vasca en lo que es el sector industrial

el nivel más inferior cuando parte uno de lo que es la educación de lo que es la formación porque a veces

la situación requiere también de echar un vistazo hacia atrás para ver de dónde partimos y partir de una situación en euskadi en la que desde hace diez años

sigue permaneciendo durante diez años en un seis por ciento cuando el cien por ciento de chicos y chicas que realizan estudios de formación profesional relacionados o que tienen que ver con las ramas de

no pasan más de seis meses en los que el cien por ciento están insertos laboralmente me parece que es un dato a tener muy en cuenta qué pasa

tan solo un seis por ciento de mujeres hacen estudios relacionados con industria cuando tienen la plena seguridad el cien por ciento tiene empleo

y eso debiera darnos qué pensar y acciones a tomar en cuenta y también debiéramos de tener en cuenta que en la actividad

menos de una mujer por cada tres hombres se dedica

y yo no voy a dar más datos porque los ha dado la señora larrion porque los ha dado la señora lópez de ocariz y porque tampoco es cuestión aquí de aburrir pero sí plenamente de manifiesto que este era un tema en el que algo

y en el que se ha podido lograr un compromiso de acuerdo y unos compromisos que yo entiendo que son importantes yo no le quitaría relevancia como decía el señor hernández

pero lo importante es dar un primer paso y que haya realmente un acuerdo y un consenso

debe adoptar el gobierno vasco y yo creo que son muy importantes los seis compromisos de un plan de acción de un plan estratégico

además que ese plan estratégico valore y vea la seguridad la posibilidad de seguridad jurídica en establecer cuotas obligatorias

haya una participación de mujeres el tema de velar por la paridad en los consejos de administración donde el gobierno vasco tenga en esas empresas participación velar porque en los foros en las charlas en los seminarios donde tenga que ver el tema de la industria

cada vez mayor de mujeres y que esto lo garantice el gobierno vasco en aquellos foros que organice a mí me parece absolutamente fundamental porque a veces

van dando y logran avances y yo creo que este es el caso de la iniciativa la igualdad que ha sido intangible durante

tratando yo creo que hoy empieza a formar parte importante de las agendas de los políticos de las agendas de la administración pública y en este tema

realmente llevar a cabo acciones están la administración pública

están los agentes sindicales y por lo tanto aquí hay mucha labor por parte de todos

y para remar en la misma dirección y yo creo que lo de hoy el acuerdo que vamos a lograr entre todas y todos en el día

aprobar para ampliar para incrementar la presencia de las mujeres en el sector de la industria vasca

como una victoria más de las mujeres una victoria que va a lograr que la brecha que existe entre géneros

la igualdad pero esa igualdad real y no tanto jurídica en la que ya estamos bastante inmersos por lo tanto felicidades a todas y a todos los que han intervenido

la unanimidad estamos todos de acuerdo en el diagnóstico y también en las soluciones hemos dejado algunos pelos en la gatera por llegar a un acuerdo quizás un acuerdo de mínimos para algunos igual de máximos para otros pero desde luego hay un compromiso real por parte del gobierno vasco en que debemos de avanzar por la igualdad y creo que hoy entre todas y todos lo hemos conseguido nada más y muchas gracias

zuzenduta dago esta adecuación oferta demanda

un estrecho trabajo de colaboración conjunta para el desarrollo de las potencialidades de los programas de actuación pública existentes o a desarrollar en aspectos como el aumento y la incorporación activa de la mujer al mercado laboral especialmente en aquellas actividades

y en aquellas profesiones más demandadas por el tejido productivo